la fiscal jefe del país vasco que comparecía ayer en la comisión de justicia

si era necesario o no mantener esta proposición no de ley teniendo en cuenta

y el contenido de la misma que tenía que ver básicamente con

estaba creada y aparecía en el boletín oficial justo del día anterior a la comparecencia tengo que decir y quiero decirlo además porque no

aquí y ahora que efectivamente mantuvimos una reunión todos los grupos en la comisión de justicia y trabajo y llegamos a la consideración de que efectivamente

el mantenimiento de este punto no tenía mucho sentido porque la fiscalía estaba creada y que igual era mejor que hiciéramos un planteamiento de una comparecencia de ese fiscal con posterioridad a la comisión pero también tengo que decir que dicho esto

después teniendo en cuenta básicamente lo que la fiscal jefe nos había planteado y el contenido de algunas de las enmiendas que se planteaba recapacité

y aunque es verdad que efectivamente tal y como dice la jurisprudencia y como dice la ley este punto podría tener una falta de objetivo sobrevenido porque se centraba básicamente la creación de una fiscalía que ya estaba pues pensé que igual era necesario que si mantuviéramos este punto que la discusión no fuera

la creación de una figura que ya estaba creada sino en lo que la fiscalía del país vasco nos había dicho es decir la dotación de medios y el resto de las cuestiones que puso encima de la mesa

dicho esto así y pidiendo desde aquí perdón y disculpas a todos los grupos parlamentarios que entendieron la cosa de otra manera

sí que entendieron lo que habíamos hablado mandamos un

no íbamos a retirar el punto y que íbamos a plantear una enmienda transaccional

y que puedo entender perfectamente que alguno no lo haya visto que no haya tenido tiempo pero intentamos de verdad hacerlo para que nadie viniera hoy aquí sin saber y sin conocer que

y el contenido de esa enmienda transaccional si esto

reconozco que puede sentar mal pero lo que también quiero decir es que he intentado

y con forma mandando la enmienda que podamos hacer este debate con esos contenidos si el debate se desvía a decir que no tenemos palabra que no tenemos credibilidad que hemos quedado en una cosa que hemos quedado en otra y que hemos hecho otra pues asumiremos esa crítica pero

es la posición que euskal herria bildu mantiene hoy aquí dicho esto esan bakarrik benetan azkenean

zentzu horretan eta betetzeko gure ikuspuntutik fiskalak esaten zituena qué vimos ayer en la comparecencia de la fiscal jefe en relación con esta cuestión nos anunció la creación de la figura pero nos dijo clarísimamente que eran necesarios más medios que eran necesarias más personas y que eran necesarios más medios para poder hacer una investigación

de este tipo de delitos nos planteó que efectivamente la figura era consecución importante además nos explicó que ella había tenido un papel en relación con esta cuestión y que era necesario que se dotara de más medios visto lo que nos decía la fiscal jefe en su comparecencia y teniendo en cuenta lo que elkarrekin podemos planteaba

entendemos y entendíamos ayer también que lo que hemos acordado como enmienda transaccional beneficia y facilita

del posicionamiento de la fiscal es decir de la dotación de medios de todo tipo y de que estos se pongan en marcha para ayudar a esta figura

komisioaren aurrean y como se quejó de que a veces la administración era muy celosa de sus cosas porque se preocupaba mucho

todo lo que tenía que ver con sus actuaciones

entendemos que la proposición que planteamos la enmienda transaccional cuando insta

corrupción o en los casos de investigación de delitos económicos de todo tipo con la investigación pues entendemos que no está de más precisamente porque ya planteaba esta cuestión

por eso nuestra enmienda tiene estos puntos básicamente la dotación de medios y la colaboración de las administraciones y una cuestión que seguramente a alguno le parecerá incluso hasta extraña que es que

tenga una unidad y que actúe en relación con estos delitos

euskal herria bildu no está por sí ni per sé

euskal herria bildu cuando la ertzaintza tiene una función y la desarrolla bien

pero la critica cuando entiende que las cosas no se hacen bien y eso no es incompatible es decir es compatible plantear que se cree una unidad o que se le dote de medios a la ertzaintza para que pueda actuar y

que en euskal herria no haya actuaciones de este tipo que nadie vea como normal ni como una cosa que se puede hacer que por el hecho de estar en una institución o de estar en un sitio o en otro puedas

de una manera concreta creemos que esa filosofía que en algunos sitios parece que es como

desaparecer y por eso estamos empujando medidas en lo que llamamos regeneración democrática para que

desaparezcan y donde verdaderamente la transparencia

de todas las personas que tienen cargos de responsabilidad o estén en empresas vaya ajustada a su verdadera actividad y no puedan lucrarse nunca ni beneficiarse

tengan que ver con enchufismo con corruptelas con desvío de fondos o con creación de empresas extrañas para poder hacer cosas distintas nuestra intención aquí hoy no es en absoluto criticar a ningún partido ni meternos con ningún partido sino simplemente poner de manifiesto que esto es así

que tenemos muy claro que nuestro país tiene que ser diferente y por eso saltándonos igual las formas que a veces son importantes reconociendo los errores que hemos podido tener flagelándonos aquí delante de todo el mundo como hemos hecho para decir que esto lo otro y lo de más allá alguno dirá ponerse la venda antes de que te peguen los demás pues bueno incluso haciendo eso

es coherente tiene sentido va en el camino de lo que se nos planteó por la fiscalía va en el camino de seguir actuando en contra de la corrupción y va en el camino de conseguir que esta lacra social desaparezca lo importante no son tanto las formas que pueden serlo

a reiterar lo que he dicho lo importante es el fondo y si en el fondo estamos de acuerdo entiendo que las formas no lo pueden tapar

mila esker presidente anderea egun on guztioi como decíamos ayer el pasado martes

había sido nombrado fiscal delegado de euskadi en materia de delitos económicos un nombramiento realizado a propuesta del fiscal superior del país vasco carmen adán

nos daba a conocer parece ser que el nuevo fiscal se encargará también de investigar los casos de corrupción

al nuevo fiscal el tiempo suficiente para hacerse con el nuevo puesto y esperando además que se le dote de los recursos materiales y humanos necesarios

porque en realidad no existen territorios que sean más corruptos que otros no es posible diagnosticar el nivel de corrupción a través del número de procedimientos penales es precisamente la falta de medios para llevar a cabo las investigaciones independientes lo que permite no detectar algunos comportamientos vinculados a la corrupción es decir es precisamente la existencia de una fiscalía anticorrupción la que permitiría que aflorasen más casos

en algunos de los casos que demuestran que el clientelismo en euskadi para algunos políticos es una forma de vida y de ahí la necesidad de tener una fiscalía delegada contra la corrupción

durante dieciséis años condenado a dos años y seis meses de prisión por los delitos de falsificación de documento público y fraude a la administración

la justicia consideró probado que modificó el contrato de ese centro al eximir a una empresa del pago del canon del ayuntamiento de casi medio millón de euros

gabino martinez de arenaza y aitor santiesteban el tribunal vasco de cuentas públicas

en un agujero de cuatro coma uno millónes de euros los aun imputados son responsables de la gestión ineficiente de alonsotegi ereiki sociedad urbanística que dirigió obras tan relevantes en el municipio

adjudicación para construir un centro de salud viviendas y un aparcamiento

la familia de la concejala de urbanismo y obras del pnv de zarautz aprovechó un caserío en ruinas para ejecutar una nueva edificación en una ubicación diferente

y se asienta además en un área rural y de especial protección

una plante de purines de carranza que se ha convertido en la gran fosa séptica

esta infraestructura se ha tragado del orden de diez millónes de euros en ayudas públicas tres coma dos de ellos procedentes

autonómica los condenados por la misma son seis administradores de la sociedad que iba a construir la planta tres ganaderos y tres políticos el exdirector de innovación del departamento de agricultura del gobierno vasco

el que fuera alcalde del valle de carranza josé luís portillo y el exconcejal josé ignacio mudo todos del pnv

ha quedado constatado por la audiencia nacional que un tal margüello

con las deficiencias de la sanidad pública vasca gestionando las listas de espera por ser amigo personal del exconsejero del pnv el señor inclán en su momento hasta el mismo consejero el señor darpón y actual consejero de salud firmó un documento asegurando su honorabilidad al final les cayó una condena mínima en parte porque el gobierno

el caso de miguel otro caso en el que el gobierno no se ha personado en la causa

con veintiocho imputados el consejo general del poder judicial lo ha calificado como el mayor caso de corrupción de euskadi el juicio se inició hace

una denuncia y que hoy se encuentra a puertas de sentencia y como

que tocan de lleno a dos pilares de nuestro estado de bienestar la educación y la sanidad pública caso jantoki siete empresas de catering pactaron durante doce años para repartirse el mercado de servicios comedores escolares de euskadi consiguiendo así unos beneficios

vasca de la competencia estimó en ciento treinta millónes de euros y que acreditó esta práctica como ilegal y el tribunal superior de justicia del país vasco la ratificó sentenciando que el gobierno vasco no solo no actuó para evitar

al igual que las ope dopadas gracias al trabajo de mi grupo y de sindicatos como

que favorece a unas personas concretas en el acceso a la función pública en las categorías de especialidad médica hospitalaria con la permisividad del consejero darpón del que hemos pedido su cese y que ha preferido buscar

denunciantes de las irregularidades hasta que se ha encontrado con un decreto demoledor de la fiscalía superior de la señora carmen adán que ayer mismo expresaba que aprecia poca

cuando es esta a la que se investiga gobierno al que por cierto no le gusta además que legislemos en materias relativas a la protección de ciudadanos y ciudadanas que denuncian corrupción en euskadi a la vista de sus criterios sin embargo en euskadi está claramente en desventaja en relación a otras comunidades como cataluña baleares andalucía murcia canarias o el país valenciano que sí cuentan con una dos incluso tres fiscalías anticorrupción es decir euskadi no ha contado con unas medidas materiales y humanas suficientes para detectar juzgar y castigar los casos de corrupción y clientelismo y tenemos dudas

para elkarrekin podemos la lucha contra la corrupción y el clientelismo es la base de la regeneración democrática la decencia política y la igualdad de oportunidades y para ello reclamamos poner todos los medios materiales y personales posibles

aquí en euskadi queremos demostrar nuestro compromiso con la calidad democrática en hacer que euskadi tenga una fiscalía delegada anticorrupción por ley y dependiente de la fiscalía anticorrupción y no de la fiscalía de la comunidad

evitar la convivencia y relación entre las fiscalías y las autoridades a las que se tiene obligación de investigar es una medida razonable que previene las presiones que pueden existir además de garantizar la unidad de criterios en la estrategia por la lucha contra la corrupción y el clientelismo por ello mi grupo en el congreso de los diputados registró

para la reforma del estatuto de la fiscalía con la modificación del artículo diecinueve punto cinco en la que pedíamos que el fiscal general del estado garantice

de fiscalía contra la corrupción y la criminalidad organizada en todas las comunidades autónomas el uso de esta fórmula en la nueva redacción responde a dos premisas

aporte los medios materiales y personales necesarios para hacer emerger los casos de corrupción que existen en todo el territorio del estado

constatada del número elevado de procedimientos como ocurría hasta ahora y en segundo lugar se mantiene la garantía así de independencia de las fiscalías delegadas a posibles presiones de los poderes locales por eso elkarrekin podemos mantenemos que la mejor opción para que euskadi tenga una fiscalía anticorrupción es tener una nombrada mediante el artículo diecinueve y que dependa de la fiscalía del estado consiguiendo de este modo garantizar la independencia de los fiscales delegados

con los que convive se mantiene la dependencia únicamente de la fiscalía

y así romper de esta forma cualquier posible contigüidad entre fiscalía y autoridades a las que se tiene obligación de investigar es una medida razonable que hace las veces de muro de salvaguarda frente a la mayoría de las presiones que puedan existir

del señor ortiz como fiscal encargado en delitos económicos y para asegurar el buen funcionamiento de dicha fiscalía en su trabajo contra la corrupción en euskadi hemos firmado una enmienda transaccional que sirva como punto de inicio

la modificación del estatuto seguiremos trabajando para que como he explicado se cuente con una fiscalía contra la corrupción y la criminalidad organizada también

efectivamente como bien nos decía la señora proponente la pérdida del objeto procesal es una de las causas por las que normalmente perdón por las que anormalmente termina cualquier procedimiento y finaliza con una resolución por la que termina ese procedimiento porque ya

llegado ayer y por lo tanto yo entendía que este debate no se iba a celebrar pero evidentemente esto no es un juicio y por lo tanto el debate lo tenemos abierto

ya que ustedes en el último momento nos han cambiado el petitum de la demanda

por otra parte que ya le adelanto con las que si estamos de acuerdo como entiendo que tiene que estar todos los grupos de la cámara porque son

y cuestiones que han sido apoyadas por la mayoría de esta cámara cuestiones de sentido común que me ha traído

que se suele utilizar mucho en los juzgados o más entre los asesores fiscales que es ese que dice que

y en este caso viendo las peticiones que nos ha traído usted encima de la mesa sobre la dotación de mejores medios económicos materiales y personales a la fiscalía la mejor dotación de medios económicos y materiales a la ertzaintza por parte de la proponente del grupo

del hombre porque no deja de sorprenderme que usted esté defendiendo la actuación que hace

y lo han hecho en muchas y numerosísimas ocasiones tanto usted como miembros de su grupo en esta legislatura y en anteriores donde han hecho quiebros impensables

materiales y personales a los miembros de la fiscalía general del estado bien sea la fiscalía del tribunal superior de justicia bien sean las fiscalías de las audiencias provinciales o bien mediante la creación de fiscalías delegadas o fiscalías especializadas para el estudio

evidentemente le reitero que no estamos en contra de que se dote convenientemente de esos medios a la nueva fiscalía que la fiscal jefe del tribunal superior de justicia del país vasco

en el boletín oficial del estado la víspera va a reforzar un papel que la fiscalía como bien ha dicho la

ya viene funcionando muy bien ella nos ha enumerado un listado

su trabajo pero como muchos fiscales que han comparecido aquí y como todos los que estamos en esta sala sabemos la actuación

de nuestro sistema judicial no siempre ha sido una actuación y una actuación que contara con los medios suficientes por eso hoy vamos a reiterar que una vez que se ha creado se le dote convenientemente de todos los medios

su correcto funcionamiento de la misma manera que instamos al gobierno a que efectivamente tal y como se nos ha dicho en reiteradas ocasiones

la investigación de los delitos económicos que no son solamente los delitos de corrupción de las administraciones públicas sino que son delitos económicos que se ponen encima de la mesa en los juzgados continuamente

y que la policía no tiene facilidad para poder llevar a cabo sus investigaciones puesto que no cuenta con los conocimientos los medios y el personal necesario y por último

que las administraciones públicas vascas han de cumplir con el auxilio judicial cuando se les requiere desde los juzgados de instrucción o cualquier órgano judicial o desde la fiscalía en la colaboración en la facilitación de documentación

bien sean ayuntamientos bien sean las diputaciones en concreto las diputaciones las inspecciones de tributos y digo que es muy triste reiterarlo porque sabemos que no siempre ha funcionado en esas condiciones y no creo que sea bueno que un parlamento tenga que estar exigiendo a nuestras administraciones el cumplimiento de la ley

vamos a suscribir ese punto porque creemos en general

siempre ha habido algunos que han ido poniendo piedras en el camino de quienes se dedican a la persecución de los delitos ese es el motivo por el que vamos a apoyar la transacción que después de tanto mareo nos han puesto encima de la mesa para debatir esta mañana muchas gracias

que se había presentado por eh bildu yo sí que he de manifestarle se lo he dicho a jone hemos tenido nuestro pequeño concilio vaticano antes de empezar esta sesión

que tenemos desde nuestro grupo por el mantenimiento de esta proposición no de ley le digo esto porque ayer

con la que pudimos contrastar directamente el nombramiento de don josé manuel ortiz como fiscal coordinador en delitos económicos que se había publicado justamente el día anterior a su comparecencia es decir el martes y que la propia fiscalía del país vasco además nos dijo que ella había impulsado esa fórmula de nombramiento pues nos reunimos todos los grupos

y creíamos que la propuesta había perdido su razón de ser

y lo que llegamos es a un acuerdo no es que entendimos mal no es que

acuerdo y el acuerdo consistía en que se retiraba la proposición no de ley en que solicitábamos la comparecencia del fiscal delegado en delitos económicos y que

que este fiscal delegado en delitos económicos nos pondría sobre la mesa realizaríamos una proposición no de ley para traerla a este pleno es decir algo que parecía desde el punto de vista totalmente lógico

que una hora después de esa lógica aplastante de ese acuerdo unánime entre cinco grupos

qué es lo que pasó cuando la señora goirizelaia bajó de la tercera planta a la primera planta es algo que me intrigó durante no demasiado tiempo también es verdad y se lo tengo que decir porque me vinieron a la cabeza

propiamente en la comisión delante de la fiscal jefe del país vasco que les dije si esto se mantiene mañana no será porque le interesaba lo que se pedía es decir el nombramiento de quien ya se ha realizado sino porque el interés de otros es hablar de su libro y no el de dotar de medios a la fiscalía usted hoy me ha bajado aquí que es muy lista

y usted ha dividido aquí la separación de papeles que no de poderes y ha dicho yo ya tengo culpa propia en mantener el punto después de haberles dicho que lo retiraba el libro que lo lea cristina que lo ha leído de pe a pa vamos se ha tirado la mitad de la intervención leyendo el libro

ni una palabra ese es el interés real que sobre este tema había aquí al fin y al cabo la verdad es que tampoco me sorprende porque esto no es la primera vez que sucede aquí solamente les voy a tener que recordar la discusión y el debate que se mantuvo en un octavo punto

allá por el mes de julio del dos mil diecisiete en aquel momento intervenían otros el señor lander el señor sémper intervenía el señor estarrona intervino creo el señor david latxaga e intervine yo misma el debate se desarrolló igual la fiscalía lo que menos importaba la cuestión el pim pam pum para poder echar hacia derecha e izquierda los casos que a cada uno le interesaba así que hoy

una enmienda transaccional ese cambio de petitum que nos ha dicho el señor ruiz de arbulo

incrementar los medios humanos de la ertzaintza y solicitar la colaboración de las instituciones con la fiscalía claro esto pues ya lo tiene acordado este parlamento

eso sí en aquel momento sin los votos ni de eh bildu ni de elkarrekin podemos aprobamos una propuesta gracias a los votos del partido popular con cuatro puntos

en euskadi la solicitud de que se dotara de medios materiales y personales necesarios para el mejor funcionamiento y la eficacia en la lucha contra el uso ilícito e indebido de fondos públicos que se implementes medidas que doten una unidad de policía judicial con dependencia real funcional de la administración de justicia y un último punto para solicitar la colaboración de todas las instituciones con la administración de justicia

la única novedad de todo esto que les he dicho es que aquel primer punto que estaba todavía sin cumplir

se dio cumplimiento al mismo y se ha nombrado un fiscal delegado en delitos económicos como saben ustedes yo tengo por costumbre leerme las memorias de la

lecciones los socialistas creemos que los informes las memorias se realizan para leerlas

más cerca del funcionamiento del servicio que se está evaluando por ello me voy a permitir y porque tengo tiempo y no tengo que leer ningún otro libro

última que se nos ha presentado relativa a los delitos económicos no es muy larga pero merece la pena la lectura

en la fiscalía provincial de gipuzkoa a iniciar los trámites para la creación de la sección de delitos económicos integrada

se destaca por los fiscales delegados de los tres territorios las dificultades técnicas en los casos y la necesidad de una formación

esta es una petición que es común a la generalidad de las especialidades y que se enmarca en una necesidad general de que el régimen de formación de los fiscales tanto en lo relativo al inicial como a la continuada sea competencia del propio ministerio fiscal

igualmente se aprecia como problema habitual en la mayor parte de los casos independientemente del territorio el enorme número de documentos que se van incorporando a las causas

y se destaca finalmente por los tres delegados la colaboración con

las haciendas forales la seguridad social la tesorería general de la seguridad social así como con los cuerpos policiales que también han ido asumiendo una mayor especialización en el ámbito de estos delitos esto y no otra cosa es lo que recoge el informe de la fiscalía

a preguntas de varios parlamentarios de profundizar en esta cuestión en esta necesidad que ella manifestaba que era la de la formación y la reflexión que nos realizó la señora

dice que una verdadera especialización de las y los fiscales a través de una formación continua específica

en estos y en otros casos que redunda en la optimización de las actuaciones de la fiscalía y que mejorará sus resultados

esto que tuvimos oportunidad de leer oportunidad de contrastar con ella no se recoge en la propuesta

en fin yo no sé si serán las urgencias mediáticas u otras razones

que las necesidades reales de las y los fiscales no son el leitmotiv real de la proposición que se trae a este parlamento

lo que ha pasado con este primer punto del orden del día de hoy como vemos es muy rocambolesco

en esta vida y en política también es muy importante tener palabra actuar con seriedad y rigor generar confianza porque esto en definitiva es ética y este es un valor muy importante en el tema de fondo del que estamos hablando el intento de erradicar la corrupción

sino más bien intentar obtener réditos políticos poniendo el ventilador y aireando supuestos casos de corrupción eh bilduk

concretamente sobre la petición de creación de una fiscalía anticorrupción en euskadi objeto concreto de la iniciativa inicial esta cámara se pronunció claramente el veintiocho de febrero del dos mil catorce en la comisión de instituciones seguridad y justicia con los votos a favor del pnv

y la abstención curiosamente del grupo hoy proponente eh bildu ustedes elkarrekin podemos no estaban nosotros en aquel momento ya manifestamos y nos posicionamos claramente sobre esta cuestión

a iniciativa de elkarrekin podemos y donde resultó aprobada la enmienda de totalidad de nacionalistas vascos y socialistas vascos con los votos a favor de pnv pse y pp y en contra también de eh bildu y elkarrekin podemos por lo tanto quizá la mayor novedad en esta materia

como decían en educación evoluciona adecuadamente al menos en esta materia se podría añadir también tarde pero evoluciona pero la cuestión

en una innegable habilidad de la señora presidenta de la comisión de trabajo y justicia a la vez que proponente de la iniciativa señaló para el día de ayer veintisiete de febrero la comparecencia de la fiscal superior de euskadi un día antes de debatir esta cuestión en pleno coincidencia

el martes veintiséis de febrero el boe publicó el nombramiento del fiscal delegado autonómico de la especialidad de delitos económicos en la comunidad autónoma

josé manuel ortiz márquez de lo que euskal herria

empezar la comparecencia con lo cual y tras el anuncio de dicho nombramiento por la propia fiscal en su comparecencia en día de ayer

habían sido atendidas y no había lugar a solicitar algo ya realizado y cumplido por ello

no es que igual casi seguro retiraba el punto no nos comunicó que retiraba el punto esto sucedió

ayer hay que matizar que tan legítimo era retirarlo como mantenerlo pero lo que nos comunicó al resto de grupos es que lo retiraba menos de una hora después no le dio tiempo a darle muchas vueltas señora goirizelaia recibimos un email del grupo

no vamos a retirar el primer punto del pleno de mañana a lo largo de la tarde os remitiremos una propuesta de transacción

puede que para ustedes sí lo sea cada uno tiene un concepto pero desde luego para nosotros y nosotras nos parece una auténtica tomadura de pelo y una vez más se evidencia que ustedes no son creíbles no son de fiar y no se puede confiar en ustedes porque señora goirizelaia podría haber dicho que lo iba a consultar con su grupo parlamentario que ya nos comentaría su decisión pero no usted afirmó que retiraba la iniciativa e iban a solicitar como comentaba la señora castelo

para que explicase sus necesidades en comisión dicho esto

es que ustedes el nombramiento de un fiscal delegado para delitos económicos o de un fiscal anticorrupción les da exactamente igual como demostraron en las votaciones anteriores que le he hecho referencia sobre esta cuestión en dos mil catorce y dos mil diecisiete me van a permitir parafrasear a nuestro compañero aitor esteban y a ustedes les da igual que nombre a un fiscal delegado para delitos económicos o que pongan un botijo con agua fresca

era soltar aquí su discurso para tratar de enfangar el terreno político y no iban a renunciar a ello

airear una y otra vez supuestos casos de corrupción los mismos casos ese era realmente su interés y más ahora que se acercan periodos electorales deben de pensar que por repetirlo muchas veces

macazaga en su intervención y aunque usted inicialmente había aplicado la lógica y el sentido común al decir que retiraba la iniciativa por ya cumplida o nos engañó o alguien de su grupo como parece ser le desautorizó y le dijo que no que ni hablar que aunque lo que se pedía en su iniciativa ya estaba cumplido lo importante no era eso lo importante era enfangar el escenario político

lo dudo pero lo que está claro es que pierden credibilidad si es que pueden perderla

nosotros inicialmente como no podía ser de otra manera íbamos a ser coherentes con lo que votamos y acordamos

y de ahí nuestra enmienda de totalidad junto a socialistas vascos que no la voy a leer y visto que el pasado martes se nombró

respecto a la enmienda de totalidad que presentó elkarrekin podemos a esta iniciativa

por esta cámara con los votos nacionalistas socialistas y populares la única novedad es que en este caso la defensora bueno quizás sería más apropiado decir la atacante

que le va cogiendo gusto a ejercer a modo de fiscal general anticorrupción

no tengo intención de repetirle los argumentos dados el veintinueve de junio de dos mil diecisiete para rechazar su propuesta

y de hecho ni los ha mencionado no le interesaba eso ha hablado de otras comunidades autónomas donde sí hay fiscalías anticorrupción se ha preguntado usted por qué dependerá del pnv quizás

de la fiscalía general del estado y según el estatuto orgánico artículo diecinueve depende del número de asuntos que lo aconseje y será que esos asuntos

la señora macazaga ya digo ni ha hablado de sus propuestas y luego con ese cambio de objeto nos presentan una enmienda transada entre euskal herria bildu

sobre una iniciativa que inicialmente era sobre la necesidad de crear la fiscalía contra la corrupción

básicamente con la enmienda del elkarrekin podemos y plantean

decía la señora gorizelaia que esto

en función de lo que había pedido la fiscalía la fiscalía lo había pedido antes de reunirnos nosotros y en función de la enmienda presentado por elkarrekin podemos las enmiendas las habían presentado en septiembre de dos mil dieciocho

esas cuestiones y lo que plantean primero en primer lugar es algo que ya se recogía en el punto primero del acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil catorce aprobado como decía con la abstención de eh bildu hoy proponente y que también estaba recogido en nuestra enmienda retirada

esto cómo se hace señora goirizelaia señora macazaga cómo se dota de más recursos humanos y materiales

no aprobar el segundo punto recogido en la enmienda de elkarrekin podemos plantea de inmediato

así como aumentar el número de agentes dedicados a su investigación con la formación y cualificación precisas dice que esto lo planteó la fiscal superior en su comparecencia

yo me he leído lo que dice la memoria del dos mil quince dos mil dieciséis dos mil diecisiete sobre la ertzaintza sobre los cuerpos policiales y por no extenderme voy a leer solo lo que dice la última memoria la presentada ayer

como los cuerpos policiales que también han ido asumiendo una mayor especialización en el ámbito de estos delitos y vuelvo a preguntar y esto cómo se hace

con palabras no con recursos económicos que salen de los presupuestos generales esos que ustedes tienen por costumbre no aprobar y que a pesar de saber que no los van a aprobar ni en sus enmienda parciales son coherentes con lo que luego propone ya que tanto unos como los otros

para los medios materiales y humanos dedicados

con la formación y cualificación precisas y luego plantean enmiendas para reducir sustancialmente las partidas de la academia de arkaute que es donde se forman y cualifican los y las agentes de la ertzaintza y de las policías locales entre otros

y luego plantean conjuntamente euskal herria bildu y elkarrekin podemos

nula señores de elkarrekin podemos y de eh bildu

de la enmienda de elkarrekin podemos y que ya fue instado también en la enmienda de totalidad de los nacionalistas vascos y socialistas vascos

y que recibió el voto en contra de elkarrekin podemos y de eh bildu coherencia plantean algo que ya fue aprobado y además con su voto

y la posición del representante del partido popular

a este juego y entra en este juego me imagino que todavía con las heridas recientes un ejemplo claro de esta colaboración

de la que desde el primer momento el departamento ha puesto en conocimiento de la fiscalía toda la documentación precisa para la investigación por lo tanto ni son coherentes con lo planteado conjuntamente eh bildu y elkarrekin podemos el veintinueve de junio de dos mil diecisiete

entre ustedes totalmente surrealista y carente de todo rigor aquella que hablaba de un censo público de condenados

ni lo que hoy plantean ha recibido su propio voto favorable cuando ha sido tratado en esta cámara por todo ello por las formas y por el fondo vamos a votar en contra de su enmienda transaccional besterik gabe

egun on berriro no sabía yo que aquí había alguien que repartía títulos

quién tiene más ética o quién tiene menos ética o como se hacen las cosas yo hay una cosa que tengo muy clara la lealtad el reconocer los errores y el dar oportunidades a todo el mundo para que reconocido el error y siendo leal porque habíamos hecho una cosa íbamos a hacer otra explicarlo en un tiempo récord tiene que ver

y con las actuaciones que cada uno hace porque si me tengo que poner a hablar de la credibilidad y de mantener la palabra puedo poner miles de ejemplos de todo el mundo

no pactaremos los presupuestos con el ciento cincuenta y cinco no tengo nada más que decir respecto a esa cuestión

me lleva a otra reflexión que creo que es importante el relato de las cosas al final es una suma de relatos y la suma de relatos

pero la cuestión principal es que aquí se está planteando algo que no entiendo cómo ahora se puede decir que se vota en contra cuando la intervención del señor nos ha dicho que por ejemplo el primer punto se aprobó ya antes y votaron a favor entonces ahí me hace a mí un relato de incoherencias me hace un relato de incoherencias

que es que estamos todas y todos de acuerdo en que la corrupción se tiene que eliminar en que hay que dotar de medios pues igual las formas reconocidos los errores de cada uno

no se suele hacer normalmente creo que eso supera las formas y creo que ya nos tiene que poner a hablar sobre el y no nos da igual que haya fiscal o no haya fiscal no nos da igual porque si nos daría igual no hubiéramos hecho una proposición en estos términos igual hay alguien que sí le preocupa

porque resulta que aquí estamos hablando de asuntos que andan dando vueltas en las cabezas de todos que se han investigado de determinadas maneras y que se nos han que se necesitan más medios pero ya no son asuntos de los que estamos hablando que parece que hay cuestiones de corrupción hay muchas condenas en estos temas hay muchas condenas entonces igual le preocupa a alguien que haya fiscal precisamente para que esto se haga de otra manera y yo

muchas más intervenciones pero bueno creo que lo que queda bastante claro es que guk nahi duguna eta zergatik planteatu dugun hori señora castelo en el grupo euskal herria bildu no hay ni gente mandando a nadie hacer nada ni lugares oscuros donde le meten a nadie para obligarle a cambiar de posición

no hay le invito a que venga le vendría muy bien que venga y así hablaríamos mucho más y a ver si podemos llegar a más acuerdos en otras cosas en las que no

como otros sitios donde sí obligan a la gente a cambiar de opinión y

no ha habido ninguna presión de ninguna clase yo he explicado por qué he reconocido que lo que ustedes dicen fue así

tiene que ver con medios con que si queremos que las cosas se hagan bien hace falta eso y no me vengan siempre con la retahíla del presupuesto a ver que yo ya sé que el dinero se saca del presupuesto no soy economista pero hasta ahí me llega

pero también sé porque nos lo han demostrado ustedes hace muy poco tiempo que el presupuesto prorrogado

sé que tienen más dinero hombre entonces no me cuenten que porque el presupuesto se ha prorrogado

no me cuenten siempre lo mismo díganme si con el dinero que hay se puede hacer o no se puede hacer y si no se puede hacer con el dinero que hay y hace falta

lo traen aquí como han traído los otros y ya lo discutiremos que si todas estamos de acuerdo en que hacen falta esos medios ustedes también porque dicen que lo votaron aunque ahora no pues entonces votaremos a favor de que esto sea así porque la realidad es que queremos que esto se acabe

yo les he dicho que no iba a hablar de partidos ni iba meterme con nadie he explicado porque y lo he hecho
el resto de la gente cada uno en sus intervenciones hace lo que le da la gana nada más y gracias eskerrik asko goirizelaia andrea

mila esker presidente andrea pues mira que yo no iba a bajar porque pensaba que en algo así todos íbamos a estar de acuerdo

enfangar o enfadar no sé qué ha dicho usted pero quiero insistir

que una fiscalía anticorrupción dependiente de la fiscalía contra la corrupción

que la que se ha planteado y es lo que nosotros hemos venido a explicar porque veo que echa de menos al señor maneiro

y que dice cosas como que toda la documentación de las

que no le ha sido facilitada con lo cual no me diga que se le facilito no la ha tenido que pedir la señora fiscal

no encontrar colaboración por parte del gobierno cuando se le está investigando estaba usted también en esa misma comisión entonces no sé qué escuchamos diferente señora castelo

mis medidas de apoyo están todas escritas primero aquí y luego en la transacción yo pensé que las había leído la letra es pequeña se las podría leer pero ya lo ha hecho el señor zorrilla

creo es lo que va a salir aprobado hoy aquí con los grupos eh bildu y partido popular y que en todo caso lo que hace es aportar medidas materiales y humanas

y que en la primera intervención había dado la razones por la que entendía a pesar del dislate lo quito lo pongo lo traigo lo cambio

el por qué el grupo popular apoyaba la iniciativa y era simplemente porque el contenido nos parecía que era correcto

alega fines oscuros en nuestra votación a favor para que salga esta iniciativa y yo lo que le he dicho

desde esta cámara el auxilio judicial la necesidad de colaboración entre las administraciones porque se da por hecho que en cumplimiento de la legislación vigente esas cosas se cumplen pero la realidad es que no es así

medios materiales ni personales suficientes para la persecución de determinados delitos económicos le he dicho antes delitos económicos entre particulares y delitos económicos realizados desde las administraciones públicas

lo sabe y por eso tenemos que pedirles desde aquí que pongan coto a esa situación y cuando resulta que

ley de protección de datos una diputación se niega a dar los datos fiscales de los imputados en un procedimiento de corrupción pues nos encontramos con que lo que se quiere hacer es la puñeta a los juzgados y no colaborar con la justicia precisamente y por eso

que hay que colaborar con la administración de justicia y usted nos ha venido aquí a decir que para eso hace falta dinero y que para eso lo que tenemos que hacer es aprobarle a usted los presupuestos

el ejercicio lamiéndose las heridas de que les tumbaron los presupuestos en esta cámara y pidiéndonos a todos que les apoyemos unos nuevos porque tampoco esa es la solución

apoyamos sus presupuestos en el año dos mil dieciocho los presupuestos salieron adelante con la abstención del grupo popular y nosotros enmendamos cuestiones en el departamento de trabajo y de justicia que no se han cumplido luego la escusa no puede ser que para hacer todas estas cosas hace falta dinero

suficiente cuando hay dotaciones presupuestarias concretas no se cumplen por qué porque al gobierno no le da la gana y porque este gobierno no tiene y ayer la fiscal jefe del tribunal superior de justicia del país vasco tuvo que reconocer que efectivamente el gabinete de comunicación que tenía una dotación presupuestaria en el ejercicio dieciocho no se ha creado porque la respuesta al gobierno es amortice usted una plaza de fiscal y dedíquelo a otra

que todavía tenga menos para tener un gabinete de comunicación lógicamente lo que no se está es colaborando con la justicia y qué ha ocurrido con ese dinero

de medios materiales o técnicos a la fiscalía no se ha ido a la caja común ha desaparecido que es lo que hacen en justicia con las partidas presupuestarias

no le quiero contar con las generales que esas ni siquiera las cumplen

vamos a apoyar la enmienda propuesta hoy por elkarrekin podemos y eh bildu

señor ruiz de arbulo la verdad es que bueno estaba ahí entretenido

no se sabía muy bien que iba a hacer pero como usted tiene una habilidad que es dar la doble vuelta hacia atrás con tirabuzón y últimamente las hace

pues tranquilamente aun a pesar de que no tenga una coma que cuestionar a un apartado pues usted pues o la vota o no lo vota bueno según baje y vea el debate bueno pues perfecto

porque hemos tenido cola en su despacho de forma previa a entrar y discutir este punto

lo que quiere y nosotros también votamos que no y votamos por una cosa muy sencilla porque nosotros no vamos a validar nunca que los acuerdos del parlamento tengan una fecha de caducidad todo esto todo esto ya está aprobado por parte de este parlamento y me gustaría saber cuál es la concreción o el aporte que con esta iniciativa hacemos hoy cuando lo que se dice es que se dote de medios materiales y humanos necesarios porque señora goirizelaia yo le voy a agradecer las disculpas porque tampoco es habitual

que se ha equivocado que ha cometido un error que ha generado además no solo confusión sino cierto malestar y que eso ha imposibilitado pues un trabajo tranquilo en esta materia

no es verdad que hayan tenido en cuenta lo que dijo la fiscal jefe del país vasco ayer porque la fiscal jefe si nos pidió algo ayer muy especialmente y el señor uria lo podrá corroborar es en la sección de menores nos dijo que hay un problema importante en la sección

de género y sobre eso en concreto si realmente queremos ayudar a la fiscalía pues no está nada aquí pero como hemos cambiado el objeto es decir si veníamos a hablar de la creación de la figura del fiscal de delitos económicos y hemos aprovechado que el pisuerga pasa por valladolid porque eso ya lo tenemos

realmente con respecto a lo que ella nos estaba pidiendo entonces claro cuando usted sale aquí y me dice le damos la bienvenida al nuevo fiscal

para saber exactamente cuáles son los recursos y necesidades que nos dice que necesita pues la verdad tampoco me parece o muy acertada esta proposición porque en delitos

se nos manifestó fue la necesidad de una formación especializada necesitan una formación especializada y nos pidió autonomía en su formación de eso aquí no hay nada que igual otro gallo hubiera cantado si en esta propuesta hubiesemos realmente traído cuestiones que pedía la fiscalía

el libro que nos han leído desde elkarrekin podemos medios que nos pedía ayer la fiscalía la unidad de apoyo fiscal es verdad con servicio de comunicación se le dota del servicio de comunicación a la fiscalía sí cómo para el tema de no amortización de plazas

señor ruiz de arbulo a través de una contratación externa no quieren una contratación externa para el servicio de comunicación de la fiscalía

segura así nos lo dijo habló de aplicaciones informáticas el avance que tienen y nos habló de la necesidad del expediente electrónico porque les facilitaría mucho su labor nos habló del problema de la dispersión territorial y nos dijo que hay problemas para cubrir la atención

eso es lo que ayer la señora fiscal nos dijo a preguntas de distintos parlamentarios y de eso aquí nada absolutamente nada

en este tipo de delitos y es verdad si eso se hace es porque se destinan recursos a ello

señora fiscal nosotros normalmente los grupos parlamentarios no tenemos dificultad en llegar a acuerdos como digo yo de contenido llegaremos a decir que usted necesita tener este medio este medio y este medio ahora eso sí

ahí tenemos alguna dificultad más y es más algunos de los que dicen que pongamos medios luego les quitan el dinero y eso es lo que pasa eso es un tema de incoherencia

es más la última vez ni votaron como no me gustó el procedimiento cojo me levanto y yo no voto en esto

estas cuestiones y la verdad elkarrekin podemos no confía en nadie

les entiendo porque tal y como están ustedes últimamente dentro no se pueden fiar ni de los suyos

de su enmienda de esta enmienda no le ha dedicado ni un solo minuto en su intervención traía tanto que leer
que sobre esto en concreto sobre el leitmotiv que supuestamente dicen ustedes que hay aquí no ha dicho absolutamente nada eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzar buru andrea respecto al señor ruiz de arbulo yo no he alegado fines oscuros he dicho unos fines muy claros señor ruiz de arbulo le he hablado

dice que la ertzaintza no tiene medios materiales ni personales para ello lo mismo puede plantear enmiendas al respecto lo dice usted

ni la fiscal superior de justicia en sus memorias ni en sus comparecencias lo dicen o alguien miente o no es verdad

del dos mil diecisiete respecto a elkarrekin podemos señora macazaga en la referencia al señor maneiro le he hecho exactamente la misma que le hice ayer quería hacérsela en público lo mismo que le dije en privado

con cariño porque mire dónde está el señor maneiro con esa estrategia política con esa estrategia política que están cogiendo ustedes el testigo creo que no me ha entendido bien no sé si no me he explicado dice que el partido nacionalista vasco nunca se ha posicionado claramente nosotros en dos mil catorce y dos mil diecisiete en esta cámara pedimos la creación de la fiscalía anticorrupción

por tanto la posición es bien clara sí sí decía enfangar

y no solo dotar ustedes plantean dotar no solo dotar cómo

quitar recursos materiales y humanos para ertzaintza y quitar recursos para la academia de formación

es importante porque en esa actitud que están tomando creo que es importante ver cómo se repara luego lo que algunos hacen o algunos dicen nadie plantea mecanismos para resarcir estas situaciones

porque señora macazaga espero que cuando finalice el procedimiento de la ope de osakidetza no sé dónde estará

pida en su caso disculpas por el daño causado daño como digo difícilmente reparable en su afán declarado de querer echar al pnv no todo vale señora macazaga y cuando alguien critica a otros tiene que tener su casa limpia y reluciente

no es su caso y eso sin responsabilidades de gestión no voy a enumerar aquí la senadora

no lo voy a mencionar porque creo que no merece la pena todos lo sabemos y acaban de nacer como quien dice

los títulos de credibilidad y ética quién reparte esos títulos de credibilidad no quiero yo asumirme esa función ni mucho menos porque no es así

que eso no se reparte eso se trabaja día a día y se gana día a día lo que yo le digo es ya sé que a usted le da igual para mí usted hoy ha perdido mucha en segundo lugar decía que usted no ha hablado de la corrupción hombre como decía la señora castelo usted es muy viva

y ha visto la metedura de pata no iba a meterse en ese jardín porque sabía que íbamos a darle en ese sentido

y que iba a airear a poner el ventilador y a empezar a repartir aquí

aceptamos las disculpas públicas y nos parece un acto digno también de mencionar y podría aprovechar

ha habido acusaciones gravísimas en esta cámara de eh bildu sobre esos casos y usted como letrada

podría aprovechar también para pedir disculpas en otro momento porque ahora no tiene opción para ello

para que esos recursos económicos existan no simplemente palabras que luego no se cotejan o no se corresponden con los hechos dice que alguien le preocupa pues no sé no sé a quién le preocupará

expusimos claramente la voluntad de que se crease la fiscalía anticorrupción no tenemos miedo y no tenemos que ocultar nada tenemos voluntad política

para personas inocentes por lo tanto nosotros vamos a votar en contra por las formas y por el fondo porque lo que hoy plantean ustedes no es coherente plantear eso cuando lo votaron en contra y se abstuvieron y nosotros sí lo votamos a favor simplemente han utilizado este micrófono para airear lo que les interesa y hacer propaganda política legítima pero

en octubre del año pasado se presentó una moción por parte de nuestro grupo que buscaba un acuerdo de mínimos en torno al futuro de la naval

lo definió como un acuerdo necesario pero insuficiente era un acuerdo institucional necesario para dar el soporte y el impulso que necesitaba

en favor del rescate de la naval cinco meses después tenemos que decir que ese acuerdo

son para cumplirlos no solo se ha incumplido sino que básicamente en estos cinco meses lo que se ha demostrado es que el gobierno vasco nunca ha tenido intención de cumplirlo y de hecho lo que ha hecho es dar pasos atrás

o el abandono de la mesa de dialogo que tenía con el gobierno central y con la plantilla aipatutako

el gobierno vasco se ha levantado de la mesa con la plantilla en más de una ocasión no ha llegado a sentarse

ha mandado a nadie de relevancia del departamento y encima ha elaborado un informe dirigido a no adquirir los activos de la naval tal y como se decía en la moción de octubre

a la jurisprudencia ni a los posicionamientos oficiales de la unión europea los pasos atrás han definido cuál es la actitud de este gobierno vasco una actitud pasiva esperando el cierre una falta alarmante y sangrante de compromiso ya que conoce la problemática de la naval desde dos mil catorce y una ausencia de liderazgo

año y medio han dejado pasar el tiempo de mala manera antes del concurso decían que había que prepararse para el concurso durante el concurso se decía que no se podía intervenir mientras estuviera la administración concursal después del concurso de alegaba a la liquidación

se espera a los despidos y a la recolocación de la plantilla han estado jugando a confundir a la ciudadanía confundiendo ayudas públicas con participación pública confundiendo con la existencia o no existencia de inversores privados

estaban pero no aparecían como del dago con los que estaban pero se me decía a mí personalmente la consejera que estaban pero que yo no los veía con los que existen pero no

y en realidad todo posible todo posible hipotético inversor privado lo que está esperando a día de hoy es lo que también busca el gobierno vasco tener unos terrenos y unas instalaciones limpios de polvo y paja sin nadie en la plantilla para poder hacer

a la que han intentado confundir asiste atónita a este espectáculo en el que un gobierno de un país renunciando a salvar a una de sus principales empresas en dificultades esta actitud del gobierno vasco esta actitud del gobierno vasco provoca una enorme decepción y creo que no solamente en nuestro grupo en la margen izquierda y en sestao esta decepción es histórica

histórica porque si la naval cierra es porque no han sabido o no han querido defenderla y esta decepción histórica se debe a que también hay una deuda histórica con la margen izquierda

su riqueza sus energías su salud y hasta la vida de muchos trabajadores y trabajadoras yo lo dije en diciembre en una interpelación al lehendakari

vasco sestao ha perdido en cuarenta años un tercio de su población

y sestao tiene una esperanza de vida de un año y medio menos que el resto de euskadi

a sestao y a la margen izquierda solo les está representando la plantilla solo la plantilla actúa en favor de la dignidad de una comarca y de todo un pueblo

porque pelean por el arraigo y por el futuro del astillero pero también pelean por los empleos

han ido a europa se han sentado con los gobiernos han encargado los informes que no ha encargado el gobierno vasco han hecho todo lo que tenían que hacer y ahora se les dice a la plantilla que son el problema que son el problema

no señores y señoras la plantilla ahora mismo es la razón de ser del astillero la plantilla ahora mismo es la solución

un ejemplo de compromiso con su empresa un ejemplo de papel activo en la búsqueda de soluciones

y un ejemplo de responsabilidad y esa responsabilidad es la que tendría que asumir también el gobierno vasco y la que tendríamos que asumir todos los grupos políticos de esta cámara

no hemos parado en este año y medio de hacer propuestas factibles realistas y contrastadas técnicamente todas y cada una de ellas y la proposición no de ley que traemos

otra más es una nueva propuesta para concretar y para actualizar el contenido de la moción que aprobamos de forma unánime en octubre de dos mil dieciocho para actualizar y reforzar el compromiso institucional en favor de la naval y en contra de los pasos atrás que ha dado el gobierno vasco en estos

nuestro autogobierno solo nos sirve si es para pelear por nuestra gente si es para salvar nuestras comarcas si es para defender

si no es para eso para qué nos sirve si no gracias eskerrik asko becerra

muchas gracias señora presidenta nosotros a diferencia

sí consideramos que está vigente el acuerdo de octubre del año pasado que aprobamos por unanimidad todos los grupos y por eso

y siempre hemos manifestado que lo importante era mantener no tanto los puestos de trabajo de la naval que estaban garantizados porque ya nos encargamos algunos de que se garantizara y se prorrogara su vuelta a navantia

sino todo el sector auxiliar y que por lo tanto la finalidad primordial que tenía que tener este gobierno

y que dé soporte a toda la empresa auxiliar y que pueda crecer y por eso

acuerdo unánime todos partíamos de la base

con socios nuevos público privada

de esa gestión y hoy usted señor becerra no nos está planteando eso usted está planteando poco más o menos que la naval tiene que seguir lo cual es a ver los ciento sesenta millónes de euros que debe

a comprar nadie o se liquida para que se pueda

y la liquidación es la liquidación de activos y pasivos de la sociedad

y mientras eso no se haga y la deuda quede a cero no podrá haber nada viable y ya

hace dos meses tres meses cuando firmamos esa transaccional unánime usted qué nos está proponiendo aquí que aunque no se haga nada

es que se recolocan en navantia si además se consigue articular algo nuevo

a lo mejor esa plantilla puede volver o parte de esa plantilla puede volver a trabajar ahí

que ver los que articulen eso que nosotros se lo encargamos al gobierno vasco pero claro es que su propia propuesta es contradictoria porque por un lado nos dice que hay que mantener la naval y por otro lado está proponiendo que se cree una empresa pública o público privada nueva esto es incompatible y ya me da igual si tiene que ser pública solo o solo privada pero es incompatible

no se puede crear una nueva me da igual pública privada o público privada

poca viabilidad real estamos planteando aquí desde esta tribuna para la margen izquierda

y para la actividad naviera o de la naval en este caso a lo mejor si nos dejamos un poco de demagogias

porque esto es lo que hicimos hace dos meses hace tres meses en este parlamento y lo que se propuso allí sigue estando vigente a alguno le gustará más algunos de los puntos que si el gobierno vasco tenía que hacer un informe

y todos sabemos cómo funciona europa y todos sabemos las sanciones que europa nos ha puesto a esta comunidad autónoma por incumplir

ya sabemos cómo funciona lo que se puede hacer lo que no se puede hacer e incluso

por eso nosotros decíamos que el gobierno vasco tenía capacidad de articular una alternativa a la situación que estaba pero es que es evidente

liquidar una sociedad y dejarla sin deuda qué socio va

por qué por qué tenemos que asumir esa deuda con los bancos

de una empresa yo me niego

y los activos que queden se podrá

que se haga cargo de esa actividad y que evidentemente por mucho que a usted le guste lo de público o hay un empresario que traiga barcos para hacer

por eso nosotros planteamos desde el principio que tenía que ser público privado por qué para garantizarle al privado

porque la administración aunque no tenga beneficios o tenga pocos beneficios se beneficia por la recaudación fiscal que se produce

y yo reitero nosotros no creemos que ha cambiado absolutamente nada en los últimos dos meses sigue sin liquidarse la sociedad con lo cual mientras no se liquide pues más tarde

adoptar soluciones y yo qué quiere que le diga me voy a limitar de momento a decirle lo que le estoy diciendo eskerrik asko damborenea jauna

volvemos a hablar del tema de la naval a alguno le parecerá que demasiado prematuramente cantaba

pues a veces veinte años no es nada y a veces cuatro meses son mucho y los cuatro meses transcurridos desde el último debate que tuvimos desde el acuerdo al que llegamos

y no ha pasado lo que sí debería haber pasado gu azken finean gaur eskatzen duguna ez da akordio berri bat la navalen inguruan

eta txostenik gabe nekez artikulatuko dugu estrategia eraginkorra esta cámara le pidió al gobierno vasco un informe jurídico que respaldara la compra de activos ese informe no se ha presentado pedíamos que lo respaldara desde un punto de vista jurídico

y ahí está la literalidad del acuerdo y ese informe no se ha elaborado por parte del gobierno vasco

un informe que desmonta la posibilidad de prestar ayudas en lugar de un informe que habla de la posibilidad de adquirir activos justificándola y respaldándola y haciendo también hincapié en los aspectos jurídico y económico

la clave de bóveda de toda la hoja de ruta a seguir posteriormente porque entendemos que este es un problema complejo desde todos los puntos de vista y que tenía que tener

un buen basamento jurídico para evitar los problemas en el futuro

entonces qué vamos a hacer cómo vamos a articular las soluciones que se pedían que se articularan si no tenemos un informe que nos dé respaldo se nos presenta un informe desganado rutinario

y para justificar las posturas predeterminadas del gobierno horregatik guk esaten dugu gobernua dela akordioa hautsi duena

una especie de persecución permanente de la plantilla a las diferentes instituciones para conseguir que les dieran audiencia también de forma desganada y a veces con una interlocución de bajo perfil que parecía más destinada a hacer pasar el tiempo a los trabajadores y trabajadoras que a buscar de forma conjunta una solución

la alternativa que había que articular por parte del gobierno vasco dónde está nosotros ni en público ni en privado tenemos constancia

ningún indicio mínimo de que se está intentando

no solo porque no se está cumpliendo el acuerdo sino porque como más de una vez hemos dicho desde esta misma tribuna

de contrarreloj y perder cuatro meses de mala manera como se han perdido

y especialmente a la plantilla y a la sociedad de la margen izquierda

intervención el único plan que parece tener el gobierno y que está siguiendo a rajatabla dejar actuar libremente a las fuerzas del mercado y mientras tanto tenernos entretenidos a todos y todas con supuestos acuerdos con supuestas interlocuciones y con supuestas gaitas porque en realidad no tiene intención de hacer otra cosa que sentarse a esperar que venga un inversos como ellos le han dicho a la plantilla el gobierno no hace barcos el gobierno está esperando

estaría dispuesto a prestar ayudas eso no es lo que se acordó aquí en esta cámara

que articulara una solución y el gobierno se está negando sistemáticamente a articular esa solución yo me imagino que cuando los trabajadores y trabajadoras

alguien del gobierno vasco quizás la señora consejera les diga aquella ya

famosa frase de rodrigo rato es el mercado amigos

y podríamos hablar de la rentabilidad porque no se trata de una empresa que no sea rentable

un futuro en un mercado competitivo sino que ha sido víctima de una pésima gestión

y de relanzarla pero parece que el gobierno entiende que hay empresas que tienen que morir porque no son rentables

ezkerraldeak la naval behar duela eta la naval errentagarria izan daitekeela que no va a ser un saco sin fondo y señor damborenea no estamos hablando de ciento cincuenta millónes y no estamos hablando de asumir la deuda lea usted la transaccional y ahí se lee claramente acudir a la fase de liquidación con una empresa pública privada

los requisitos de la normativa europea porque no gracias al gobierno que no lo ha hecho pero gracias a los trabajadores sí tenemos un informe de un bufete especializado que nos dice que se puede hacer esto

a los altos funcionarios de la comisión a ver si había algún problema dónde están las respuestas de la comisión europea

y que me lo pongan por escrito qué puedo hacer y qué no puedo hacer no lo han hecho porque el gobierno vasco no se ha dignado a dirigirse formalmente

su intervención que era no mojarse en la naval por eso yo creo que es el momento de dar un punto de inflexión hay titulares

vive sus últimas horas yo a pesar de que el tema sea dramático quiero introducir una pequeña nota de humor como suelo hacer siempre esto de las últimas horas me recuerda a aquella frase de mark twain que decía los rumores sobre mi muerte han sido ligeramente exagerados

son exageradas porque la naval tiene futuro porque la naval puede tener futuro si se articula la intervención público privada que esta cámara pidió y que hoy pedimos que se materialice

sino queremos que esos acuerdos sean una auténtica hoja de ruta para salvar el astillero eta guk eskatzen duguna txosten hori egitea eta eskatzen dugu txosten hori egitea adituen partetik es que este gobierno y es que no me resisto a volver a repetir

cuando trató de explicar bastante malamente por cierto o justificar el informe que había hecho su gobierno

bienvenidogs para que la gente venga aquí con sus perritos de vacaciones

y no es capaz de contratar a la mejor asesoría a la mejor consultoría

y tienen que ser los trabajadores con sus escasos recursos los que vayan a europa los que encarguen los trabajos el gobierno no quiere

por eso digo que a partir de este momento eh bildu se pone en el lado de la exigencia y da por no cumplido el acuerdo y exige al gobierno que desarrolle y que cumpla ese acuerdo decimos que no al ere y no décimos que la plantilla siga trabajando en la naval décimos que siga trabajando en euskadi

que a esas edades es una auténtica fractura emocional social

de liquidación con una empresa público privada cosa que está comprobado que se puede hacer

ya pidió en su momento ez naiz luzatuko

buenos días de nuevo señor casanova a mí en este asunto no me entra ni una coma de humor

saben ustedes señor becerra señor casanova que este parlamento siempre se ha pronunciado de forma unánime en apoyo a la naval de sestao no les voy a recordar todas usted tampoco ha querido solamente mencionaré la última vez hace escasos cuatro

pero hoy se va a romper esta trayectoria el ansia de protagonismo que tienen algunos actores los futuros electorales con los que algún otro

pues hacen que la demagogia del discurso las falsas esperanzas la manipulación de la información hará que este panel que tengo aquí detrás cuando se ponga en sentido votación no aparezca monocolor no sea verde el verde de la esperanza no

y no seremos nosotros los socialistas los que tengamos que dar explicaciones serán ustedes los que tendrán que hacerlo nosotros sabemos que la solución a la naval no se va a dar

por muy aplaudida que sean sus intervenciones la solución a la margen izquierda

al astillero de la naval la solución a sus trabajadores a los de la empresa auxiliar vendrá de la persistencia en las gestiones en las reuniones en las conversaciones que sin tanta algarada sin tanto foco mediático y sin tanto relumbrón

tiempo nosotros lo que no vamos a avalarles es que los acuerdos de este parlamento tienen fecha de caducidad el señor casanova tiene experiencia conmigo con esto porque luego vamos a hablar otra vez en negociación colectiva se lo voy a tener que repetir ya lo he tenido que decir para temas de fiscalía

las cosas vuelven una y otra vez si lo hemos acordado porque hay que reinsistir

no es el futuro de la naval y en eso señores no van a tener nuestra complicidad no van a tener la complicidad de los socialistas para esa devaluación señor becerra

sino por el propio gobierno que como representante público que usted es no debe de tergiversar ni de contribuir a la ceremonia de la confusión y le tengo que decir que sinceramente después de su intervención en la comisión

a los pelos comas e hilos de aquel informe y de la intervención que ha tenido usted hoy aquí yo empiezo a dudar de que sus intenciones en este tema después del manoseo al que está sometiendo el sufrimiento y la angustia de los trabajadores de su familia y de nuestra comarca pues no es muy sincera

aquí se echaron ustedes en cara la consejera y usted quién iba a pasar al historia por este tema lo que sí tenemos claro los socialistas es que nosotros

en los que usted nos quiere enredar no nos vamos a entretener

le saque el que tengo ahí guardado y que ustedes no leen de forma completa no le voy a dedicar ni un segundo no voy a hacer comparaciones de las declaraciones desde que este tema

en prensa no le voy a recordar el origen de publificamos al cien por ciento que no señor becerra ni un segundo de mi esfuerzo va a ir a ello y por una razón muy básica

es que todo eso no ayuda a la solución de la empresa de la naval no ayuda a sestao no ayuda a la comarca de la margen izquierda para nada los socialistas

pero mucho más discretamente buscando las complicidades necesarias para lograr alternativas viables sólidas realistas

que desde luego no se van a lograr por mucho que ustedes agiten esta tribuna resulta muy fácil muy fácil y muy sencillo y muy barato muy barato

venir con propuestas que ya me gustaría a mí que nos pudiéramos sentar y me explicarán ustedes cómo hacemos algunas de las que aquí me ponen

le está ayudando el señor casanova desde eh bildu no le va a dar una solución a la naval y mucho menos a nuestra comarca a mí no me interesan sus necesidades pero

y cuando estamos fuera de esta tribuna y qué rabia me da

el pasado mes de octubre y que se las voy a recordar entonces yo les decía estamos en tiempo de descuento es cierto pero tan cierto como que existe una voluntad sincera y férrea de todos los agentes implicados de los trabajadores de los partidos de las instituciones y de los gobiernos de remar todos en la misma dirección

junto con el resto de grupos de esta cámara para instar al gobierno vasco a que redoble los esfuerzos para garantizar el futuro de esta empresa

de mi comarca sabemos que están preocupados y reconocemos que están ocupados en darles una solución pero les pedíamos les pedimos que desde la legalidad

pero señor becerra gracias a usted hoy no podré terminar mi intervención así y eso
se lo apunto en su haber eskerrik asko

egun on guztioi en su pelea por ser la izquierda de este país da lo mismo si la izquierda vasca la medio pensionista o la izquierda izquierdosa

de dar pasos para tras llegar a acuerdos al día siguiente

lo mismo ocurrió la pasada semana que tras un año del acuerdo sobre la participación del gobierno en determinadas empresas tractoras en clave de país

elevaron el tono y las exigencias para lo que había sido un acuerdo estallará por los aires esta vez solo cuatro meses vienen a romper la unanimidad alcanzada el veintidós de octubre aquel acuerdo que supuso un trabajo de pacto entre grupos parlamentarios y que cuajó en lo que por cierto deseaban los sindicatos de la naval que no era otra cosa que la unanimidad

inicial de elkarrekin podemos reitera al inicio de cada frase lo que suscribimos por unanimidad en octubre para luego

para instar al gobierno a nuevas tareas así cuando decíamos que había que poner todo los medios al alcance del gobierno podemos nos aclara que se deben adquirir

elkarrekin podemos se descuelga instando a que en caso de que no exista un inversor privado de referencia crear una empresa pública para la gestión de la actividad productiva de la naval toma ya y lo mismo que pide que se haga el informe que ya se ha hecho

en elaborar el plan de viabilidad para lanzar la actividad de la naval

un plan de viabilidad previo a conocer quién puede ser el inversor privado

en un plan hecho por otros y por último de remate aparte de pedirle ex novo al gobierno que oferte la compra de los activos de la draga que estaba construyendo la naval acaba pidiendo que se consignen las partidas correspondientes en el presupuesto dos mil diecinueve ay el presupuesto dos mil diecinueve ese que ustedes pudieron haber aprobado para dotar de todo ese dinero a la naval y salvarla y se negaron con qué presupuesto quieren ustedes que el gobierno vasco dote esas partidas aunque también les voy a decir

jurídicamente poco de lo que señalan se podría hacer y ustedes lo saben

para que nos diga lo que ya sabemos conclusión hoy acuerdo y mañana sube el listón para ver si les pillo despistados o

y a la mañana siguiente arrepentimiento en cualquiera de los casos

y luego está la enmienda de eh bildu más comedida eso sí pero en la que no se entiende cuando afirma

el informe que se le encargó al gobierno relativo a la posibilidad de que el propio gobierno se hiciera con los activos de la naval existe entre otras cosas porque ya lo han criticado

reprocharon que lo había hecho un funcionario existiendo gabinetes de expertos de más nivel por el exterior lo escuché miré fijo a los que estaban y al ver que a nadie se le caía la cara de vergüenza me fui todavía más preocupado si cabe si se encarga un trabajo al exterior

y si se les encarga a los funcionarios les parece fatal que no se lo paguen a una consultora externa

purita oposición no ideológica ya me gustaría que tuvieran ideas no no son la oposición de la oficina de pesas y medidas de paris son oponerse

quieran escuchar pero nunca que no se ha hecho la única posibilidad de acuerdo en esta materia tengo la sensación es que al tiempo de solicitar el informe nos soliciten

podemos ir avanzando en la misma enmienda de eh bildu se apelan a otras dos instancias de la resolución unánime que dicen no se han hecho y que son poner todos los medios a su disposición incluida la inversión económica directa y articular con el sector privado una alternativa para la viabilidad para eso hay que volver al propio informe que dicen no estar hecho aunque lo han leído

y que cualquier entrada de capital público solo puede darse con un plan de viabilidad y con la participación privada incluso y ustedes también lo saben ya en mayo del dos mil cuatro la comisión consideró ilegales las ayudas a los astilleros hubo que devolverlas y aquello con qué acabo con la quiebra de la sepi

que para reflotar la propia sepi hubo que vender los astilleros

al sector privado es decir la propia naval su origen es la devolución de unas ayudas fraudulentas si todavía no se ha podido avanzar más en algunos temas es porque las condiciones necesarias no se han producido

a su alcance para evitar el cierre para siempre de la naval e intentando articular junto al sector privado esa alternativa que le pedimos la consejera arantxa tapia comento en esta cámara que tiene contactos

y escuchado posicionamientos favorables de otras administraciones públicas vascas pero ustedes saben que en tanto no se solvente la liquidación de la empresa

los pasos para retomar su actividad están bloqueados y por tanto

no es por el gobierno sino porque el ere se está retrasando a lo que la amenaza de judicialización añada seguramente el ahondamiento del proceso

ante la proactividad de la otra izquierda competitiva están ustedes controlándose no hay más que leer la transacción cuando saben que lo posible se ha hecho y el resto se está trabajando

de inversor privado elemento imprescindible y lo saben pero siempre señor casanova su enmienda es mejor era mejor que la proposición original

aunque ya he visto que la transacción pues

está clara porque tengo la sensación de que ha cedido mucho hacia otros ámbitos saben ustedes que el gobierno no puede hacerse con la naval

y del plan de viabilidad que lógicamente debería liderar el inversor privado y saben ustedes que el gobierno lo está intentando otra cosa

vuelvo a decirlo que la situación judicial y la amenaza de alargarla para el futuro

incertidumbre e inseguridad jurídica creo que estamos saciados del asunto que lo que se puede hacer está más que claro y que solo con la de un inversor privado se va a poder avanzar porque saben

que la voluntad de las administraciones públicas vascas es clarísima y es la de acompañar la de buscar y convencer a inversores privados solo insinuar que el gobierno no lo intenta

puede seguir reiterando el debate e ir elevando la solicitud pueden romper los consensos logrados pero con esa

salvo intentar trasladar a los trabajadores la falsedad de que ustedes son los que de verdad se preocupan por el tema cuando se lo puedo garantizar quien de verdad está trabajando para buscar soluciones viables y legales que no imaginativas y ficticias

sin mítines sin ruido como hay que hacer las cosas con la naval y con cualquier otra empresa en su situación lo suyo en ruidos e insensatez sin lógica ensombrecer simulando

con la sola voluntad y el solo dinero público cuando ustedes saben que no y lo saben si no

en esta cámara si este es el artillero de platino e iridio

si esta empresa es el fundamento económico de euskadi y con dinero público en exclusiva se arregla que esto último lo he escuchado en esta cámara muy sencillo haber aprobado los presupuesto con las partidas suficientes

porque el gobierno y el grupo nacionalistas vascos no diferenciamos entre empresas cuando se trata de salvarlas de reciclarlas

mientras que ustedes cada día teorizan más desde la subjetividad dedicándole muchos más medios y crispación a la naval que a cualquier otra empresa en su situación que las hay lo dicho en su pelea por liderar el flanco de babor de este país

ante similares situaciones en diferentes empresas vascas puede ser miedo a pactar con el pnv

electoralismo ante las fechas que nos encontramos que ya les vale utilizar este problema o una mezcla en cualquier caso una actitud

la imaginación exagera la razón subestima y el sentido común
modera pues ya saben sentido común muchas gracias eskerrik asko tellería jauna

nos venga ahora a intentar confundir entre los activos y los pasivos

se va a la liquidación a adquirir los activos no los pasivos

esa confusión me gustaría que no fuera deliberada porque deliberada es la que ha hecho el gobierno hasta ahora con ese tipo de cosas y usted no puede caer en eso por lo tanto si hablamos de demagogia intentemos aplicar un poco de sentido común en eso porque usted en la última comisión dijo que no quería ver convertida

lo dijo qué pasa que sí se puede tener a piqué a soria o a morenés como ceo de navantia sí verdad por qué

porque una es industria española y otra es industria vasca usted en octubre firmó un acuerdo en el que decía que se instaba al gobierno vasco a poner todos los medios disponibles a su alcance incluyendo la inversión económica directa

económica directa usted señor tellería

y que de alguna manera ha hecho todo lo que se podía hacer

cuál era el terreno de juego mire durante año y medio le hemos pedido al gobierno vasco que nos diera la carta de respuesta que le dieron a la comisión europea cuando preguntó se interesó por las ayudas

en darnos esa carta bien por fin la tenemos veintiocho de enero el ministerio

de españa ante la unión europea mandó a bruselas el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete es decir menos de un mes después de que

y dice textualmente se comunica en primer lugar que el ministerio de economía industria y competitividad no ha acordado ni hay previstas

de medidas financieras por medio de fondos públicos o bajo control público

en segundo lugar se remite anexo informe de contestación del gobierno vasco que confirma la ausencia de ayudas otorgadas por las autoridades regionales el gobierno vasco afirma que la empresa construcciones navales del norte

hace año y medio tanto el ministerio como el gobierno vasco sabían que no había ayudas públicas y habían respondido a la comisión europea que no había ayudas públicas y durante año y medio nos lo han ocultado a la oposición a esta cámara y a la sociedad y han estado jugando con las famosas ayudas para arriba y para abajo para arriba y para abajo y me equivoqué en octubre que la actitud del gobierno vasco era dubitativa inconsistente débil y cambiante no es cierto la hoja de ruta es nítida es deshacerse de la plantilla para adjudicar los activos al mejor postor es no hacer nada hasta que este astillero

y por eso necesitan tiempo por eso piden tiempo porque lo que quieren

acabe como ya tienen claro que tiene que acabar pero no van a contar con nosotros nuestra actitud señora castelo ha sido coherente fuera y dentro y hemos estado año y medio haciendo propuestas

ellas usted dice que son discretos su silencio

atronador ustedes han perdido la oportunidad en este mismo debate y en otros anteriores de poner de manifiesto

como por ejemplo dejar plantada a la ministra con la plantilla mandando

un alto cargo de quinto escalafón o de sexto escalafón

y ustedes ante eso callan y otorgan

tener la capacidad de volver en el tiempo o traer en el tiempo aquí a gente como pablo iglesias o facundo perezagua

a la margen izquierda hacían temblar a toda la burguesía de bilbao para que vieran lo que están haciendo ustedes con el apellido socialista por toda la margen izquierda y desde luego

yo le adjudico a usted el papel y ya está acabamos el debate le voy a recordar solo un par de cosas porque usted ha citado altos hornos altos hornos se cerró

cuando nosotros llegamos al gobierno de españa en el año mil novecientos noventa y seis había que recolocar que era el compromiso del gobierno de españa anterior a seiscientos

y se recolocaron todos en la margen izquierda por el gobierno del pp así que lecciones a nosotros no nos dé ninguna esto de venir a confundir oiga yo no me confundo nada en su última frase

claro quieren despedir a toda la plantilla para luego repartirse los activos al mejor postor qué pasa

hay que saber cuáles son los activos y todas las deudas las de los bancos y las deudas con los trabajadores quién está engañando aquí a quién

venir aquí a hacer demagogia porque incluso les podría poner a parir a ustedes

o qué claro pero nosotros no estamos aquí para eso

señor casanova yo no necesito ni espero

si en este parlamento dependiéramos de lo que nos dice el gobierno vasco de que podemos o no hacer en este caso o en cualquier otro caso

ni necesito estar pidiendo informes continuamente en temas para eso estamos

nos informamos y sabemos las cosas ustedes eran los que querían que el gobierno vasco haga un informe a nosotros

nos parece muy bien que lo haga no necesitamos ningún informe ni del gobierno vasco ni de nadie para saber que hay que crear una empresa nueva

y si hay que crear una empresa nueva hay que liquidar la antigua así que dejemos de hacer aquí demagogias y confusiones a los trabajadores de la naval

hay que liquidar la sociedad señor casanova

inversión directa en la empresa vamos a ver pero por favor qué tendrá que ver ser accionista

que se encarga de en este caso de contratar barcos y hacerlos en tiempo y en forma

el accionista puede ni estar sentado en el consejo de administración

o qué pasa el señor galán es el mayor accionista de iberdrola o qué de qué estamos hablando

si de verdad nos importa que la actividad en la margen izquierda continúe si estamos a otra cosa

y en lo que estábamos dos años antes cuando conseguimos aplazar otros dos o tres años que los trabajadores tuvieran la garantía de poder volver a navantia si se cerraba

es que la actividad naval en la margen izquierda que por cierto era lo que acordamos en el punto primero unánimemente

pasa por el mantenimiento de la actividad del astillero de la naval

y de su industria auxiliar que era lo principal

ahora bien si la liquidación se retrasa

la posible si al final se retrasa mucho y los posibles activos que quedan se van devaluando ellos solos por sí mismos a lo mejor resulta que al final efectivamente es muy complicado

a lo que inevitablemente es ya el cierre de la naval eskerrik asko damborenea jauna eh bildu casanova jauna zurea

se ha metido solo con el señor becerra en relación a la transaccional y yo reivindico que se meta también conmigo porque quiero reivindicar

de esa transacción en la cual hemos introducido ideas importantes y por tanto me hago responsable de lo que ahí se dice y además con satisfacción porque creo que es una buena propuesta para mejorar las cosas

sino con la frivolidad en todo caso si no vamos a acabar como en el nombre de la rosa proscribiendo la risa y el humor la bruja avería decía aquello de

que desee que se cierre la naval yo creo que absolutamente todo el mundo que está aquí querría que la naval siguiera abierta yo no creo que nadie esté obrando abiertamente para hacer el mal no

con una filosofía política que en este caso va a conducir a esos malos resultados y ese alguien es el gobierno vasco

y otro en privado verdad porque en público todos defendamos la naval defendamos la naval pero en privado

hay quien cree que no tiene ninguna solución hay quien cree que eso es el normal transcurrir de las cosas porque abordan el problema desde su óptica liberal y cree que es el mercado el que lo tiene que arreglar desde la perspectiva del mercado esto no tiene ninguna solución y esa es la posición del gobierno vasco

porque no pensando teóricamente así tiene que justificar a un gobierno que está actuando así

en todo caso será su problema y no eluda responsabilidades yo también

porque aquí si leemos la transaccional se hace una serie de propuestas concretas con las que se puede estar de acuerdo o no

podemos discutir no me creo en posesión de la verdad absoluta pero demagogia ninguna porque son propuestas que entendemos que son factibles

y con el informe jurídico encargado con los trabajadores si ustedes creen que no es así digan por qué no pero no acusen de demagogia porque demagogia es por ejemplo

manifestaciones de los trabajadores darles palmaditas en la espalda y luego no

pero luego por detrás no estar haciendo lo que se debe hacer y la cuestión del informe hombre

o sea quien sea un informe que se pide en su literalidad para que

la operación de adquisicion por parte de las administraciones públicas de los activos de la naval eso no puede confundirse de ninguna de las maneras y desde la buena fe con un informe del gobierno vasco que se titula informe en relación al posible otorgamiento de ayudas a construcciones navales del norte si construcciones navales del norte va a desaparecer y va a ser liquidada de qué gaitas estamos hablando de ayudas a cnn

si eso ya sabemos que no es lo que se pedía no es el resultado es que el informe no responde en absoluto a lo que se pedía y el informe es crucial porque es una cuestión que requiere un blindaje jurídico y es un blindaje jurídico que nos tiene que dar garantías de que lo que estamos haciendo no va a topar con la unión europea como decía el señor becerra

que les haya mandado la comisión europea las consultas que haya hecho el gobierno vasco a la comisión europea sobre esta cuestión porque yo no las he visto si las hay no las he visto por tanto estamos hablando de sobreentendidos o somos más papistas que el papa y estamos ya diciendo antes de preguntar que la comisión europea nos va a prohibir cosas que a otros países no les ha prohibido y que el informe jurídico encargado por los trabajadores dice que no está prohibido hombre vamos a ser serios que no estamos aquí hablando

modestamente hemos tratado de aportar las que entendemos que pueden contribuir decía

en lo que no ayudáis en tener un marcador en verde para dar una carta blanca al gobierno

eso es lo único que está haciendo y no nos sirve de nada tener el marcador me da igual tenerlo en verde o en colorines

que haga lo que tiene que hacer para salvar la naval y si el marcador aquí en verde supone dar un aval

ayudaría tener un informe jurídico que respaldara la adquisición de las acciones ayudaría poner en marcha o tener un informe que desde un punto de vista económico y de viabilidad industrial haga un planteamiento de futuro a la naval ayudaría o no ayudaría

en el proceso de liquidación ayudaría o no ayudaría ayudaría buscar socios inversores tanto públicos como privados

y también seguridad jurídica ayudaría o no ayudaría de eso es de lo que estamos hablando y ustedes se escudan en la demagogia

muchas descalificaciones generales hablan de lo que no hemos venido aquí a proponer pero desde luego se escabullen de la realidad del problema y es que el gobierno ha decidido que solo un inversor

para eso desde luego que no cuenten con nosotros nosotros vamos a seguir presionando para que el gobierno tome la iniciativa cree esta empresa y no es cuestión ahora no me hablen de presupuestos y no presupuestos la señora tapia ha venido aquí muy ufana diciendo que existen los recursos

de una inversión exorbitante amaitu mesedez lo que hace falta es voluntad política y capacidad de articular esa alternativa y si ustedes vienen hoy aquí hoy a dar el respaldo a un gobierno que se está negando de facto y que está desobedeciendo este mandato parlamentario y no está creando ni articulando esa alternativa será su problema pero con nuestro grupo no cuenten eskerrik asko casanova jauna

los socialistas tenemos mucha experiencia y el cuerpo muy hecho a la batalla al aguante y a la persistencia y no nos levantamos así como así de una mesa por ninguna cuestión que pueda pasar y sabe usted por qué porque cuando uno rompe un acuerdo cuando uno se levanta de una mesa

los socialistas llevamos en este tema usted acaba de llegar acaba de llegar a mí es que en este tema

veinte años casi de mi vida en participación pública al lado de la empresa

me molesta sobremanera la demagogia y la confusión con la que ustedes plantean este tema aquí y no equivoque ni les equivoquen a ellos los que rompen el acuerdo son ustedes con esta propuesta qué es lo que ayudaría me decía el señor casanova qué ayudaría ayudaría ayudaría usted sabe lo que ayudaría

ese informe pagado siete páginas son malas veintiuno son perfectas

de memoria las conclusiones en una hoja y media y todas las conclusiones todas pasan todas por un inversor

entonces aquí nadie ha mentido claro que nadie ha cambiado de posición claro que lo han hecho y lo han hecho al albur de que empezamos con una cosa usted fue mucho más prudente el señor becerra menos

él no se había enterado todavía escuchaba lo que le viene de atrás escucha y encima no lo y a mí me dan ganas a veces y me dice mi grupo cálmate

y lo que vale es esto salir aquí y decir igual otros deberíamos de parar de hacer lo que estamos haciendo igual deberíamos de dejarles el paso a ustedes

la organización hacemos el informe las consultas previas a la unión europea que dice su informe que tenemos que hacer

si esa es la solución pero como luego me calmo y luego me duele y me importan y no quiero además engañarles y por eso no les digo lo que sé que no les puede decir lo que sigo haciendo es de forma callada

para que nadie se levante de una mesa para que se sigan coordinando determinadas historias que se están pidiendo para que se flexibilicen determinados plazos que necesitan

para saber si podríamos o no podríamos después retornar y cómo habría que hacerlo si tenemos algún escollo legal

en todas esas nos estamos preocupando en este momento los socialistas ya sé que no les importa les interesa esta tribuna

no me interesa para nada me molesta que a usted no le importe que esa pantalla se ponga

porque cuando es monocolor a ellos les da fuerza para seguir insistiendo allá donde tienen que ir a esas altas esferas que ha dicho el señor becerra que fue una invitación del grupo parlamentario de podemos en el parlamento europeo para que fuera un sindicato que tan siquiera todo el comité de empresa a reunirse con los parlamentarios de allí

esa es la gran gestión que se ha realizado desde podemos si no hace falta que le hagan la pregunta lo que necesitamos es llevarles el plan

de las instituciones públicas gobierno vasco diputaciones forales

a ver señor casanova no tengo inconveniente en dirigirme a usted pero me he dirigido más al señor becerra que sabe

y además porque considero que él es el autor intelecto electoral

no rompía en el fondo la unanimidad mantenía exactamente el acuerdo que habíamos hecho lo único que pedía usted era decir que se estaba retrasando el gobierno

pero lo ha convertido en otra cosa ha entrado en el juego

no voy a entrar a seguir discutiendo más porque hay también otras maneras de solucionar el conflicto y de entrada de entrada no quiero decir

si uno habla con el foro marítimo vasco que es el clúster de la industria naval de euskadi pues nos están comentado

la semana pasada me decían que en estos momentos no hay en euskadi disponibilidad ni de ajustadores ni de soldadores es decir que parece que por ese lado que es cierto que algunas industrias habrán tenido que hacer algunas restructuraciones las están digiriendo

se está avanzando de hecho ustedes saben también lo contó el otro día la señora tapia el gobierno vasco por un lado

a volver a navantia que nadie está deseando que tengan que irse lejos

ad hoc para esas personas que no quieren irse o para los que no tienen ese derecho para irles buscando un acomodo laboral es decir se está trabajando

tenerlo desde esa visión positiva y no solo pensar que a base de las arcas públicas podemos solventar un conflicto que en general habían generado si es acaso

que eso es lo que no se ve claro que tenga que solucionarse de una sola manera y en ese sentido creo que hay que ser positivo

en todos los ámbitos independientemente de que esté buscando un inversor privado y miren no sé tenía alguna nota más pero

por qué ha renunciado a algunas cosas como la compra de la draga en la transacción porque no es contrastado ni factible o por qué

no lo sé quiero decir simplemente me ha entrado esa duda porque usted

y en una interpelación a la señora arantxa tapia le dijo empezó su intervención diciendo que altos hornos cerró por la crisis del petróleo

babcock wilcox cerró por la globalización que eran inevitables

y no sé por qué de repente me ha venido y que claro que en cambio la naval es por la ambición capitalista y me ha venido lo que mi compañero el señor grajales el otro día les decía

que los lehendakaris habían sido muy buenos cuando habían pasado veinte años bueno se ve que los cierres de empresas de la margen izquierda

pero a mí no me ha gustado esa reflexión que hizo usted y en cualquier caso nosotros con nuestra enmienda hemos pensado que la del partido popular que se va a votar antes que la nuestra es más sencilla y resume perfectamente lo que pretendíamos que era mantener la unanimidad del veintidós de octubre el acuerdo del veintidós de octubre con lo cual

voy a emular a mi amigo aitor esteban que lo

lo hace siempre pero ayer le escuché y me pareció y le diré

y a las otras tampoco y en cualquier caso hoy se verá con esta votación que aquí

es ganar con los votos muchas gracias eskerrik asko tellería jauna amaitu denez eztabaida bototara jarriko dugu elkarrekin podemos

señora presidenta señorías consejeras buenos días

venezuela vamos a volver a hablar de ese gran país otra vez aquí en el parlamento vasco

ese gran pueblo con quien este país el país vasco tiene

tantas relaciones históricas familiares de acogida comerciales muchas relaciones

saludar a las y los representantes de la comunidad venezolana en euskadi y desde luego trasladarles desde mi grupo desde el grupo popular

este momento político este momento que hemos querido que sea para el acuerdo y para avanzar en el camino de la

lo que nos trae aquí esta iniciativa mi grupo presentó la proposición no de ley que hoy debatimos en el momento en que el señor juan guaidó elegido legítima

interino de venezuela con el fin de favorecer su reconocimiento y de ayudar a ese país a liberarse de la dictadura y la opresión del régimen de nicolás maduro

recordando también un acuerdo que hubo en este parlamento el acuerdo parlamentario de hace dos años prácticamente del cuatro de mayo del dos mil diecisiete en el que esta cámara en aquel momento el cuatro de mayo del dos mil diecisiete ya manifestó su preocupación

y en concreto y quiero recordar exigía al gobierno de venezuela la inmediata liberación de todos los presos políticos en aquel caso también nos referíamos incluso

trasmitíamos nuestras condolencias algo que tenemos que seguir haciendo a los familiares de los fallecidos en las manifestaciones por la represión brutal del régimen de nicolás maduro y pedíamos desde aquí investigar esas muertes

en aquel momento de las competencias detraídas a la asamblea nacional y que la constitución le atribuía

solicitaba al gobierno de venezuela que los organismos internacionales humanitarios del sistema de naciones unidas y regionales de américa pudieran visitar en condiciones normales el país para colaborar con las autoridades para determinar el alcance de la crisis humanitaria

establecer los medios precisos para revertir la carencia de medicamentos alimentos esenciales de eso hablábamos hace dos años también exhortábamos también al consejo

de la unión europea sobre venezuela diseñando planificando acciones concertadas para garantizar la solución de la crisis humanitaria los derechos humanos

luego me referiré también a los acuerdos en el parlamento europeo

apoyar la mesa de diálogo y de negociación que se había puesto sobre la mesa en aquel momento jugaban

en aquel momento y bueno este parlamento lo recordaba y recordaba sus esfuerzos y denunciaba desde luego

decisión que buscaba evitar las elecciones y la expresión del voto democrático de la ciudadanía de la manera además que lo hacía está claro que

viene bien desde luego para enmarcar hoy esta nueva fase hoy juan guaidó es reconocido

por el congreso de los diputados como ya hemos visto por sus sesiones y sus acuerdos

en una amplísima mayoría por la mayoría de los países de la oea desde luego por las democracias occidentales en su gran mayoría es decir ese tema

reconocido esa capacidad de presidente interino de venezuela para convocar unas elecciones

viene desde luego a justificar que hoy hablemos también de ese tema nosotros presentamos una iniciativa

ha dado los pasos que tenía que dar hoy tenemos que hablar de más cosas todavía por eso el fondo

clara y fundamental la resolución del parlamento

sobre situación en venezuela resolución en la que se analiza e identifican

desde luego donde se identifica el principal problema que es

que rodea institucional a ese dictador efectivamente

el texto del parlamento europea es una resolución

de la situación y de los problemas que tiene venezuela de una manera extraordinaria efectivamente empieza considerando que las elecciones que se celebraron el veinte de mayo del dos mil dieciocho se llevaron a cabo y estamos hablando de democracia fundamentalmente que es por donde queremos

para el desarrollo de un proceso creíble sin que se respeten el pluralismo político la democracia la transparencia y el estado de derecho que la unión europea junto con las organizaciones regionales y países democráticos no reconoció ni las elecciones ni a las autoridades que surgieron de ese proceso ilegítimo eso está

de ese reconocimiento que tenemos que dar a juan guaidó desde luego ese texto

que el diez de enero del diecinueve nicolás maduro usurpó ilegalmente el poder presidencial

el orden constitucional eso es algo que también está muy claro y que esa resolución y nosotros la traemos aquí y la queremos recordar en relación con esa cuestión ha quedado bien clara

de la asamblea nacional juró como presidente interino de venezuela de conformidad con la constitución

seguía considerando y seguía haciendo alusión esa resolución a los

manifestaciones a las víctimas mortales a los cientos de heridos

a las víctimas que sigue habiendo constantemente a las violaciones de los derechos humanos como consecuencia de actos de violencia y de represión contra las protestas sociales las redadas ilegales las detenciones arbitrarias

la estigmatización la persecución de activistas de la oposición la detención de periodistas ayer mismo veíamos como un periodista de un medio mejicano era retenido era secuestrada sus artículos en relación con maduro es decir ese es el día a día de lo que pasa ahí eso es lo que recordaba además esa resolución

además recordaba además cómo el parlamento europeo y su

recientemente a la oposición democrática y a los presos políticos en venezuela es algo que está patente que también se ve donde está el apoyo recordaba también la tasa de inflación que supera el mil seiscientos cincuentacero por ciento es decir algo

se está hablando en relación también con las circunstancias económicas que vive el país y desde luego lo que decía y a donde vamos a parar es que la resolución de la eurocámara reconoce el voto de la amplísima mayoría

de la republica bolivariana de venezuela de conformidad con la constitución venezolana habla

algunos discuten esa circunstancia pero en cualquier caso con arreglo a la constitución venezolana pedía esa declaración que para nosotros ha sido fundamental en este desde el reconocimiento por parte de españa hasta ahora en relación con lo que

de la comisión europea junto con los estados miembros seguir adoptando el proceso de decisiones posición firme unificada que reconozca a juan guaidó como presidente interino que organice las siguientes elecciones pedir a los miembros de los estado miembros desde luego en ese sentido y hacia una condena enérgica de la represión

de la violencia que han causado asesinatos heridos manifestaba esa solidaridad las sinceras condolencias con los familiares entroncamos con lo que fue nuestra posición

de esas detenciones de periodistas que cubren la situación de venezuela la expulsión de tantos observadores internacionales de tantas personas que se citan allá para hablar con la constitución y son inmediatamente expulsados de allá recordemos recientemente la expulsión de varios eurodiputados de venezuela por parte de una manera arbitraria por parte de las autoridades con el fin de impedir además que haya contactos

lógicamente se mueve en el ámbito de lo dictatorial de la represión es decir son elementos importantes que fundamentan

profundizar en el apoyo y hacerlo en todos los ámbitos posibles y también en esta cámara esta cámara este parlamento que ya ha demostrado

en momentos complicados con declaraciones institucionales con posicionamientos políticos su apuesta por la democracia en ese país hermano y desde luego pues lo queremos hacer y lo tenemos que hacer en ese sentido hemos

fundamento ha sido la enmienda de totalidad que el grupo nacionalista vasco y el grupo socialista presentó es decir una vez presentada nuestra proposición no de ley efectivamente había que buscar un punto superador ya de esa realidad

no de ley y se ha encontrado en un texto que hemos sido capaces de firmar y que

ese texto dice que el parlamento vasco al igual que la unión europea bueno ahí están diferentes posiciones

está la comisión la señora mogherini con sus declaraciones con sus comunicados bueno

un proceso político que lleve a unas elecciones libres y creíbles y apoya a la asamblea nacional como la institución democráticamente elegida

exige que los derechos civiles libertad seguridad sean respetados y aplicados al conjunto de la ciudadanía

los peligros que una dictadura amenaza en este caso a esos miembros

la atención sobre esa situación también hablamos de algo fundamental que es el eje fundamental del acuerdo que es que el parlamento vasco apoya a juan guaidó apoya a juan guaidó presidente de la asamblea nacional democráticamente elegida para que lidere un proceso de transición que desemboque

y por otros observadores internacionales ese es el elemento de la cuestión

parlamentario desde la soberanía popular desde este pueblo hermano en relación con venezuela del apoyo a juan guaidó vuelvo a decir para

hablamos también como punto importante de que el parlamento vasco inste a las fuerzas armadas y a los diferentes cuerpos policiales armados a que respeten los derechos humanos y aseguren la integridad y la seguridad de todas las personas lógicamente esas llamadas igual que lo hacia la resolución del parlamento europeo igual que lo hacía antes también

lamentablemente permanentemente en esa exigencia de que se esclarezcan los asesinatos de que cesen las violaciones de derechos humanos

indiscriminadamente no eso tiene que seguir constando y como quinto punto desde luego el parlamento vasco reitera su profunda preocupación

y exige que toda la ayuda humanitaria sea urgentemente trasladada a su población para aliviar las crueles privaciones que sufre diariamente

algunos cauces de solidaridad pero lógicamente todo es insuficiente pues hay que seguir también desde nuestra

en relación con neutralizar también la crisis humanitaria a parte de la brutal crisis política que vive ese país está claro que

de tomar un acuerdo de estas características que pedimos al resto de grupos que se sumen esta declaración de apoyo a juan guaidó por parte del parlamento vasco

el país vasco ha tenido y tiene muchos vínculos como recordaba al principio con venezuela vínculos que ni chaves ni maduro

con este debate y con esta posición política y parlamentaria y con la iniciativa que presentamos vínculos que queremos reforzar

y las libertades públicas ese es el acuerdo que yo presento hoy a esta cámara y desde luego espero que sea

egun on venezuela decía el señor barrio estamos ante el enésimo debate sobre

venezuela qué tendrá me pregunto si estamos debatiendo en un parlamento

o si maduro no tiene alguna importancia que este parlamento o cualquier otro que no sea el pueblo venezolano piense sobre maduro diría que no que no lo tiene

ha sido es y será el propio pueblo de venezuela

país victorias menos dos veintiséis o veintisiete elecciones con un sistema electoral abro comillas transparente y claro

en palabras del expresidente de estados unidos y peligroso y conocido comunista

por lo que parece claro curioso que nadie de la oposición

también cambiaron hacia gobiernos progresistas otros países de américa del sur

ni europa aliados y títeres de estados unidos en política internacional podían permitir

en desarrollo social y económico inclusivo y dos integración regional independiente de lo que dijeran los estados unidos y por ejemplo y una declaración muy importante que hay que sacar hoy aquí declarar a américa del sur zona de paz que fue la celac la que lo declaró y la que estados unidos está violando en este momento

el golpe de estado en honduras el golpe policial en ecuador el encarcelamiento de lula que sigue en la cárcel el golpe de estado judicial a dilma rousseff el golpe de estado a lugo en paraguay

y venezuela claro un país con problemas más que evidentes con una polarización que hasta ahora se ha resuelto por la vía de las urnas un país curiosamente que tiene una de las mayores reservas de petróleo de oro y de otras materias primas del mundo pero además tiene un gobierno no acolito de los estados unidos y eso molesta molesta mucho

ese golpe a la patronal a la iglesia a aznar y también a unos cuantos vascos y vascas y de ahí además también las fuertes sanciones y embargos económicos al pueblo de venezuela que no al gobierno que al que afecta es al pueblo

treinta y cuatro millónes de dólares retenidos en compras de medicamentos cientos de millónes de euros de pagos a medicamentos retenidos y por ejemplo un avión de iberia que hace quince días volvió con doscientos mil

y claro que hay una crisis económica muy grande en venezuela y que hay problemas en el día a día en venezuela estuve allí hace meses

para saberlo y hay infinidad también de errores por parte del gobierno como en cualquier parte del mundo claro que lo hay claro que lo hay pero cuál es nuestra respuesta ayudar o hacer un bloqueo económico que encarezca aún más los productos básicos para hacer una rebelión para alentar una rebelión

esta es la manera que tienen ustedes señores del pp del psoe y del pnv que han apoyado este tipo de declaraciones en otros parlamentos

el veinte de mayo hubo unas elecciones presidenciales libres y legítimas isiltasuna mesedez

libres y legítimas con la presencia de más de doscientos observadores internacionales dos de ellos por cierto miembros de esta cámara y el señor

la mesa bloquearon una invitación del consejo nacional electoral a este parlamento para acudir a esas elecciones como observadores internacionales y ahora debatimos bajo qué

no lo hemos hecho qué legitimidad tenemos para opinar

y mi opinión personal importa cero en este tema

hablaron y además hablaron de unas elecciones que eran fruto de unas negociaciones en la republica dominicana ante el gobierno y la oposición lideradas por el presidente rodríguez zapatero y otros presidentes de latinoamérica

quién fue el que se levantó en el último minuto quién fue quien se levantó en el último minuto después de haber alcanzado un acuerdo para hacer unas elecciones presidenciales

y otra parte de la oposición y no lo digo yo lo dice zapatero ahí está la hemeroteca para verlo y fueron además elecciones fruto de un acuerdo de garantías electorales entre los candidatos de la oposición que sí decidieron presentarse

y aquí están las firmas de los cuatro candidatos presidenciales acuerdo de garantías electorales esto es el acuerdo de garantías electorales

presentarse a las mismas también ese día se realizaron tres elecciones en venezuela otras elecciones en venezuela elecciones regionales en tres estados ganó la oposición no ha visto ninguna reclamación en contra de ese resultado doble moral doble vara de medir

iba a haber problemas sabíamos que iban a intentar desconocer el gobierno de maduro y vino la farsa de la autoproclamación en la calle del diputado juan en un procedimiento totalmente irregular y aparte ilegal y oye curiosamente en treinta minutos el campeón de los derechos humanos donald trump y el subcampeón bolsonaro van y reconocen a guaidó vaya primeros dos amigos del supuesto presidente encargado

barrio y además veinticinco de enero el señor donald trump nombra

de estados unidos para asuntos de venezuela ya saben quién es este señor no que financió a la contra

a irán el asesor de seguridad nacional de reagan el arquitecto de la guerra a irak

este tipo o tipejo es quien está a cargo de una operación de ayuda humanitaria y digo así

no hay proceso legal de ayuda humanitaria según el derecho internacional porque ni es imparcial ni es independiente

a objetivos de carácter militar no lo digo yo lo dice la onu cáritas y la cruz roja

si trump y abrams y otros quisieran aliviar el sufrimiento del pueblo de venezuela

económicas no estarían utilizando la carestía económica como arma política no lo estarían haciendo pero es que quieren utilizar y esto es lo grave de todo esto ese sufrimiento como excusa para sublevar al ejército cosa que no ha pasado y justificar una intervención

están usando irresponsablemente al pueblo como carne de cañón porque no habrá toma del poder por parte de la oposición sin la fuerza

de venezuela no habrá toma de poder por parte de la oposición sin fuerza lo repito eso es lo que dice capriles señores del pp del psoe y el pnv saben que reconocer a guaidó es una irresponsabilidad

y de diálogo para evitar un derramamiento de sangre lo ha dicho por ejemplo craig faller el jefe de comando sur del ejército de los estados unidos hay dos maneras

o lo sacamos como marcos eso es promover la democracia la pregunta es

es por qué hacen esto ustedes ahí están los resultados de las operaciones para defender

en libia en siria en yemen con armas vascas que es una vergüenza que sigamos permitiendo el envío de armas vascas a yemen y este parlamento

mientras los refugiados de esas guerras se ahogan por miles en el mar mediterráneo por eso

qué van a hacer si hay un golpe militar o una intervención extranjera en venezuela lo van a apoyar

para qué ha servido este reconocimiento al proceso farsa de la presidencia

de guaidó es una decisión irresponsable errónea además porque había una alternativa y está en marcha todavía

pacífica del conflicto o también seguir las palabras del secretario general de naciones unidas antónio guterres diálogo diálogo diálogo mediación mediación mediación

los principios de la carta de las naciones unidas no injerencia no intervención respeto a la

apostar por el diálogo y la mediación y cuál es nuestro lugar cuál debería ser nuestro lugar apoyar el diálogo lo otro es apoyar un golpe eso es la única disyuntiva que tenemos

con quince años con apenas quince años con el no a la guerra de irak

qué hacen el partido nacionalista vasco y el partido socialista obrero español con los del trío de colón apoyando un intento de golpe en venezuela si los mismos que dirigieron la invasión de irak están ahora al mando de la operación guaidó me pregunto irónicamente por si no se nota

zarata egiteko ekartzen duzue proposamen hau esan duzu hemos querido que sea para el acuerdo

los socialistas tenemos muchas razones para tomar posición en relación con lo que está sucediendo en su país y hoy voy a expresar entre otras muchas

la primera es una razón de carácter internacional de solidaridad internacional y de respeto y defensa de los derechos humanos algo que nos concierne al conjunto de la humanidad y que obviamente a nosotros nos motiva y nos lleva a

país donde en estos momentos no se están respetando los derechos humanos en segundo lugar queremos apostar por evitar cualquier acción armada generalizada que venga del interior

todas las posiciones políticas y toda la defensa política que estamos haciendo al respecto

del diálogo sobre la base de tratar de establecer unas garantías democráticas que permitan

y por tanto estamos y estaremos en contra venga de donde venga de cualquier iniciativa que recurra a las armas en tercer lugar

posicionamos porque la ayuda humanitaria entre a venezuela por exigir que entre esa ayuda humanitaria cuando es absolutamente necesaria

para el conjunto de su población en cuarto lugar queremos defender y proteger a los

las consecuencias de todo lo que hasta ahora he comentado y además queremos recuperar

y queremos recuperar un mínimo de calidad de vida para los ciudadanos y ciudadanas de venezuela por tanto es oportuno que

hoy uniéndose a la comunidad internacional alce también su voz y tome posición para influir en una salida al grave problema que tiene en estos momentos el país de venezuela hablar de venezuela hoy es hablar inevitablemente

de nicolás maduro sus logros son los siguientes dividir y enfrentar a la ciudadanía meter en la cárcel a la oposición destruir

impedir la ayuda humanitaria manipular y amañar la justicia y el ejército propiciar inseguridad criminalidad contrabando saqueos corrupción

reducir las libertades políticas y civiles llevar a un país rico a la pobreza hacer sufrir hasta el infinito a su población venezuela necesita

democrática una transición con participación internacional una transición que

a dar la palabra al conjunto de los ciudadanos para que ellos allí resuelvan democráticamente la configuración de unas instituciones que estén

de no democracia y que a su vez puedan recuperar la calidad de vida que en otro tiempo tuvieron venezuela no es un problema ideológico no es un problema de izquierda y derecha en esto momentos tampoco es un problema de guaidó o maduro

venezuela es un problema de si transita de la enfermedad a la salud de si transita de la delincuencia a la seguridad o de si transita de la persecución

y cuando aquí se intenta coger citas datos países situaciones y hacer muchos paralelismos es porque hay muy poco interés por hablar de venezuela porque si en este país hubiera un presidente de gobierno en este

votado por el noventa y nueve por ciento de la ciudadanía y que hiciera solamente el diez por ciento de lo que está haciendo hoy maduro

de la ciudadanía pero en venezuela se permite que desde el año dos mil quince haya tres millónes y medio de personas

salir de venezuela para poder vivir han tenido que salir de venezuela o han tenido que huir de venezuela para poder vivir para poder defender su integridad física

allí con el salario mensual de un trabajador es imposible comprar cinco kilos de patatas para todo un mes esta es la realidad económica de venezuela

venezuela tiene más de cuatrocientos mil millónes de dólares fugados del país es los últimos años tiene un ochenta y siete por ciento de la población que vive en la pobreza

que tiene como se ha dicho las mayores reservas de petróleo del mundo y no tiene gasolina para sus ciudadanos pero además sus ciudadanos no tienen dinero para comprarla

es un país hoy donde la actividad más desarrollada es la mendicidad es lo que se ve permanentemente y eso no se puede ocultar y eso no hay demócrata que lo pueda tolerar no hay demócrata que lo pueda esconder y no hay demócrata que lo pueda disfrazar sea de lo que sea el reparto de la ayuda humanitaria que hemos visto en estos días el reparto de la ayuda humanitaria se ha convertido en cinco muertos en doscientos heridos en cincuenta detenidos

y en los demás que han tenido que dar la vuelta porque no permitía el gobierno con el ejercito que se diera a los ciudadanos alimentos y medicinas que tanto lo necesitan ese es un gran logro de maduro

y que ha dado la vuelta al mundo hoy de cómo está la situación en venezuela esto decía antes no va de maduro o guaidó

no va de izquierda o de derecha esto va de dictadura o de democracia y por lo tanto los socialistas estamos estaremos siempre con la vida y la libertad estaremos con la democracia

con todos los ciudadanos y ciudadanas sin excepción de venezuela y muy especialmente con quienes más están sufriendo esta situación me gustaría que nadie

hacia otros problemas otros conflictos y otras situaciones dramáticas que también se viven que también cualquiera de ustedes cuando quieran pueden tomar la iniciativa de traer

una proposición no de ley aquí y podemos hablar de yemen podemos hablar de lo que quieran bueno la agenda la eligen los grupos de la oposición y un grupo de la oposición ha traído venezuela y hablamos de venezuela y venezuela no se puede tapar con otras cosas y añadiré una cosa más

de este parlamento de la que formo parte no vetó el viaje a venezuela lo que dijo es que no pagaba el viaje a ningún parlamentario para ir a unas elecciones amañadas tramposas y antidemocráticas

lana justizia janaria botikak y se puede afirmar rotundamente que todos los estándares de vida que guardan relación con las condiciones de venezuela han empeorado notablemente en los últimos años ha sido la razón por la cual más de tres millónes de habitantes según la onu más de cuatro millónes

han debido de salir del país simplemente para poder sobrevivir

la pobreza es tremenda y sigue aumentando día tras día y como decía antes falta de todo faltan medicinas

y sanitarios más básicos y alimentos de primera necesidad y además la población que aún vive en venezuela debe de enfrentarse

la primera es que vive en un régimen que no respeta los derechos humanos y no lo digo yo lo dice la comisión de derechos humanos de la onu además tiene que sobrellevar una tremenda delincuencia de las más altas del mundo y por terminar lo que han recordado tanto el señor barrio como

que descapitaliza cualquier patrimonio personal por muy modesto que sea

ya que es mucho más fácil comprar hoy que pagar el doble o el triple mañana

patético cada día más patético y si la situación de venezuela no fuera tan trágica yo diría que grotesco prohíbe la ayuda humanitaria se permite quemarla en la frontera y mientras su gente no tiene ni para comer

no voy a hablar otra vez más de la inflación pero es que además de esa hiperinflación que

en índice de homicidios en el mundo después de siria que es un país que

pero es que además el veintidós por ciento de los homicidios

el veintidós por ciento de los homicidios hasta hace poco

y para pagar la deuda le ha regalado a precio de saldo su petróleo y los recursos minerales y como rusia tampoco es tonta y business es business para el señor putin rusia ha vendido doce mil millónes de dólares en material militar señor zatón a venezuela

en los últimos años tanques aviones y armas ligeras eso sí como siempre a cambio

y explotación de las minas de oro y de diamantes como lo decía hace dos semanas también el señor putin ha decidido que venezuela iba a ser la punta de lanza de rusia en américa latina y de paso

para que la aviación rusa pueda utilizar las bases en venezuela en venezuela falta de todo

venezuela y que ha dedicado toda su vida a los pobres además de ser rector de la universidad católica andrés bello

relevaba en una entrevista en el año dos mil diecisiete que seis exministros chavistas habían informado que el régimen

de dólares al país esto no lo decía el padre ugalde

antiguos ministros chavistas hoy por hoy tenemos antiguos directivos de pdvsa petróleos de venezuela sociedad anónima que están procesados en andorra por

y otros exdirectivos también están procesados por blanquear en dubái ciento veinticuatro millónes de dólares de comisiones ilegales eso es el régimen de maduro

venezuela se está empobreciendo y entre los años dos mil trece y dos mil diecisiete ha perdido el treinta y ocho por ciento de su pib pero el año pasado

eso es la venezuela del señor maduro

que controla el poder judicial y como le parece poco quiso anular los poderes de la asamblea nacional legítimamente elegida en el dos mil dieciséis pero eso sí controlada por los

y por eso instábamos en la mayor brevedad posible a que se celebraran en venezuela estas elecciones

o de una observación internacional y también pedíamos por ello porque tenemos miedo a la violencia

cuerpos policiales y las milicias bolivarianas y células bolivarianas que tienen armas por todas partes utilicen la violencia contra su población y eso es lo que no queremos el pacto de lima ya ha dicho que no iba a utilizar la violencia que la rechazaba

y pedimos que las fuerzas armadas la policía y los cuerpos de seguridad defiendan a su población

y cómo no vista la situación de venezuela que la ayuda humanitaria que es perfectamente legal señor martínez zatón llegue cuanto antes no se queme en las fronteras

y pueda llegar a donde tiene que llegar a la población que se muere de hambre que más

por tanto votaremos la enmienda transaccional que hemos negociado grupo popular

muchas gracias presidenta y sí también con brevedad al señor martínez zatón y a la señora etxebarrieta

nosotros estamos muy orgullosos de este acuerdo pensamos que es un acuerdo importante en este momento político estamos muy orgullosos de este acuerdo alcanzado y yo quiero además agradecer al señor aguirre y al señor su facilidad su disposición el hecho de que hayamos podido hablar de estas cuestiones

está claro que yo no me he puesto en contacto con ustedes porque las enmiendas de totalidad el sentido de lo que querían expresar era opuesto a lo que nosotros queríamos hablar lo querían eludir desde luego de una manera

el señor martínez zatón en su enmienda o no clara porque no aparecía por ningún lado el hecho

a juan guaidó es decir en su enmienda de totalidad no aparecía nada de eso hablaba de otras cuestiones que bien que pueden ser

el acercamiento también podía haber estado por su parte

martínez justificar a maduro como lo hace usted y haciéndolo escondiéndose detrás del pueblo venezolano

reprimido que vive con miedo que vive con todas las privaciones

de eso de esa situación para justificar a maduro usted además señor martínez zatón usted representa

la extensión de maduro en euskadi usted lo representa claramente usted representa la extensión de maduro en euskadi

en españa de su ideología de sus características políticas de sus apoyos y eso es lo que representa usted o sea que

el mérito de justificar lo injustificable usted lo ha hecho claramente lo ha hecho aquí desviando la atención en otros conflictos en otras circunstancias y desde luego no reconociendo

la situación que vive ese país el golpe de estado permanente en el que vive ese país por parte de sus dirigentes de maduro como antes de chávez y ahora y ahora

o sea la luz se ha visto con la actitud valiente

decidida del presidente de la asamblea nacional venezolana

política la luz democrática la luz de un futuro se despeja algo el futuro desde luego está muy complicado todavía el señor prieto el señor aguirre han hablado de las cuestiones que pasan a día de hoy pero hoy hay una luz

reconocer los gobiernos de francia de españa de reino unido de alemania de suecia la unión europea o sea

en hacer una referencia fundamental a una gran resolución aprobada el mes pasado ese es el elemento fundamental además ya trata de meter el miedo y habla de las intervenciones militares el recurso a las armas

el que hace recurso a las armas recurso a las armas contra su pueblo todos los días

eso lo sabe usted es decir cómo puede hablar del miedo a que haya una intervención nadie ha hablado de eso aquí nada de eso hemos hablado aquí

para desviar la atención para no meterse en el meollo de la cuestión para desviar y para justificar no sé qué riesgos no sé qué nada de eso estamos hablando con las leyes con las resoluciones

la unión europea los países de eso estamos hablando a día de hoy y

no desvíe la atención de esa manera

no es la realidad lo que es una irresponsabilidad señor martínez no es respaldar a guaidó usted ha dicho es una

es una irresponsabilidad desde luego seguir encubriendo

eso es la irresponsabilidad desde luego de aquí lo denunciamos pero el pueblo venezolano es el que la padece

estamos desde luego al lado como he dicho de esas declaraciones de esas resoluciones de esas democracias

señor martínez zatón lo que es un sarcasmo

es un insulto es llamar elecciones democráticas

eso es un insulto a la democracia desde luego ya lo ha dicho bien claro algo tan objetivo como en este caso como una mayoría

europeo en relación de cómo fueron esas elecciones no fue un proceso creíble no se respetó el pluralismo político la democracia la trasparencia el estado de derecho es decir por eso no se reconoció

que eso está ahí es decir no sé cómo puede usted llamar elecciones democráticas

ayer se pronunciaron en el congreso de los diputados un gobierno que oprime a su pueblo

y en el respeto del orden constitucional que emana de la voluntad popular

y desde luego compartimos esas declaraciones hechas en el congreso de los diputados muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

señor barrio el consejero de seguridad de trump amenaza a

a ver mesedez isiltasuna por favor silencio y creo que harían bien

que harían bien perdón de repasar las palabras que yo he dicho y hemos hablado de crisis económica en venezuela y de todos los problemas de venezuela hemos hablado de que intentar no venir con ideas preconcebidas

aquí la disyuntiva es cómo lo solucionamos lo solucionamos con sanciones lo solucionamos con bloqueos lo solucionamos con ahogar a un pueblo que bastantes problemas tiene

económicas o lo resolvemos con diálogo diálogo diálogo diálogo y diálogo y todas las veces que usted quiera y mediación mediación

en su transacción ni una sola mención a un mecanismo de diálogo puesto en marcha por uruguay por méxico por bolivia que apoya además

ni una sola mención qué curioso a la iniciativa de diálogo quién dijo que no a la mediación del papa

eso es la realidad eso es la realidad y hablan de geopolítica

intentaré seguir a pesar de las interrupciones del público por cierto habla el señor aguirre

china y de rusia de geopolítica bueno podemos hablar de geopolítica yo abogo por un mundo multipolar y democrático

claro que el gobierno de maduro hace acuerdos con china y con rusia qué ha dicho john bolton

sería deseable que las empresas de estados unidos pasasen a controlar los yacimientos petrolíferos de venezuela ahí está ahí está el cariz democrático

lo demás son todo fuegos de artificio y teatro de una farsa

por sí sola y elecciones tan presidente que es juan guaidó tan presidente que es juan guaidó en la constitución de venezuela un presidente encargado tiene una serie de días

ni tanto presidente porque no hay ninguna convocatoria de elecciones ha habido una propuesta de elecciones elecciones legislativa diciembre dos mil diecinueve

no aquí lo que importa es derrocar a maduro entonces ya no nos importa una democracia la libertad

señor barrio yo tengo mi opinión sobre nicolás maduro y sobre el proceso venezolano y no la he dado hoy aquí y no la he dado revise un poco las

ser ni contrario ni a favor de maduro para hacer la intervención que estoy haciendo yo en este momento

y además es pública pero es que no hace falta no hace falta tenerla aquí estamos hablando de elecciones libres de elecciones democráticas de mediación y de diálogo

en el otro y ayuda humanitaria vamos a ver lo que hubo el otro día en cúcuta

que estamos encima llevando un problema a esa zona de colombia que bastantes problemas tiene también colombia

que hacen falta cosas en venezuela hagamos un proceso para que eso llegue por qué iberia con una orden todavía no muy clara del gobierno de españa

a venezuela por qué esa ayuda no se deja entrar y se intenta hacer el show de cúcuta el otro día un show por cierto bastante no tengo la foto claro había un concierto con un montón de gente allí

supuestamente a favor de la ayuda humanitaria a venezuela qué curioso la foto de la derecha en latinoamérica

a casi más de un kilómetro del resto del pueblo para los vip y el resto del pueblo venezolano

ejemplo de esos barrios que perpetúa la derecha en venezuela ese es el ejemplo del concierto por tanto

la opinión importante de este debate es la de los venezolanos y desde la comunidad internacional por cierto es mentira que el conjunto de la comunidad internacional apoye a guiadó

la oea no consiguió los votos no los consiguieron no los consiguieron qué pena pero no los consiguieron

hay varios países que están bloqueando eso por suerte por suerte porque son países responsables que no están apoyando golpes de estado por tanto termino diálogo diálogo diálogo y mediación y apoyo al mecanismo de uruguay de méxico para promover

todo lo demás será seguir alentando a este proceso golpista

y por agentes externos en venezuela democracia diálogo mediación volvemos a decirlo que no hace falta
estar en un lado ni en el otro estamos hablando de diálogo eskerrik asko y respeto a la democracia eskerrik asko martínez zatón

sobre el reconocimiento de jefes de estado extranjeros ez daukat denborarik aipatzeko

eta amaituko dut barrio jauna esan duzu guk aurkeztu duguna que es opuesto a lo que usted proponía pues si el diálogo es

muy claro cuál era el objetivo de hoy gracias eskerrik asko etxebarrieta

muy brevemente señor martínez zatón

al señor maduro maduro hace dos meses dijo que en su gobierno había mucha corrupción esto dijo el señor maduro

en un país democrático un presidente de gobierno que dijera que en su gobierno hay corrupción

que sabe que conoce que existe la corrupción en su gobierno que haga una confesión de delito en su gobierno cuánto un gobierno democrático en cualquier lugar donde la democracia

no duraría absolutamente nada entonces la pregunta es para usted cuánta corrupción se necesita en venezuela

apoyar su grupo político al señor maduro cuánta corrupción se necesita cuánta hay que certificar cuánta miseria tiene que trasladar a la población

deje de apoyar al señor maduro conteste a eso conteste a esto porque es de lo que estamos hablando estamos hablando de venezuela y claro que hay una solución para venezuela la solución pasa además solo y exclusivamente por ellos

porque ellos decidan y eso solo se puede hacer en unas elecciones libres sabe lo que son unas elecciones libres unas elecciones libres son aquellas donde no haya exclusiones aquellas donde la oposición no está en la cárcel

el concepto de unas elecciones libres las que no se pudieron dar en mayo del dos mil diecisiete o del dos mil dieciocho en venezuela

la oposición también decidió no participar unas elecciones libres unas elecciones democráticas unas elecciones donde la junta electoral y la justicia

de favorecer a quien está gobernando o mal gobernando un país como el señor maduro porque no hay ninguna duda y hay demasiada información al respecto de hasta dónde llega la manipulación de la justicia en

con tal de favorecer todo aquello que ha querido conseguir el señor maduro sin tener el apoyo de la ciudadanía como así se demostró en las últimas elecciones

maduro no es el presidente querido por la mayoría de la ciudadanía de venezuela

de una mayoría de los venezolanos lo obtuvo de una minoría

en unas elecciones amañadas en unas elecciones con exclusión sin oposición esto es a lo que hay responder porque claro tendrá que haber

y tendrá que haber el mismo nivel de democracia y la misma regla de democracia aquí en alemania en francia o en venezuela o es que ustedes a cada país

de democracia que no tiene nada que ver lo de un país con otro este es el problema

y bildu sabe perfectamente y todo el mundo sabe perfectamente que el problema del diálogo para consensuar unas elecciones

por consenso y me da igual que a través de la onu o a través de la mesa de montevideo

me da exactamente igual ojalá se pudiera hacer unas elecciones consensuadas pero la pregunta es cuándo un dictador quiere consensuar

este es el problema de maduro cuando alguien quiere perpetuarse bajo su dictado se convierte en un dictador y el diálogo es lo que más

maduro está en el poder porque hizo trampas en las elecciones de mayo del año dos mil dieciocho violó los derechos humanos

encarceló a los líderes políticos y mató a los manifestantes

a esta tomadura de pelo la comisión de derechos humanos de la onu denunció

y nadie reconoció la validez de las elecciones ni en la unión europea

ninguno de los veintiocho estados miembros de la unión europea reconoció la validez maduro es un impostor reconózcanlo nik ez dut ulertzen hemen

los amigos de maduro son la república popular de china

y erdogan que tanto quería denunciar la señora etxebarrieta

porque él es un nostálgico de los golpes hace pocas semanas estaba festejando la intentona del golpe militar de hugo chávez frías donde por cierto murió gaizka etxearte un gran vasco los militares están en todas las partes del poder maduro ha militarizado venezuela

controlan doce ministerios y seis estados de venezuela y el ministerio de alimentación que fue creado en el año dos mil cuatro para paliar la hambruna que había en venezuela ha recibido sesenta mil millónes de dólares para compra de alimentos pues no hay ni alimentos ni dinero

lo han robado la fuerza armada nacional bolivariana está al mando

constructoras firmas agrícolas seguros bancos y fábricas de vehículos y de ropa

un conglomerado de trescientos veinticuatro empresas y filiales y qué ha hecho venezuela está produciendo la mitad de lo que producía hace cinco años está arruinada y está descapitalizada

le voy a leer lo que decía rafael ramírez ex vicepresidente

maduro ha violado la constitución ha abusado de su poder se ha convertido en un gobierno autoritario

y ha actuado con violencia pero además ha sido un incapaz en la gestión gubernamental en particular económica

el eje fundamental de nuestra economía y el noventa y seis por ciento

y dice maduro no solo está actuando al margen de la constitución sino que ha cometido graves violaciones de derechos humanos y actúa ilegalmente

en base a unas elecciones diseñadas por él y para él tiene que salir porque está destrozando el país y lo va a seguir destrozando se le acabó el tiempo llevo cinco años engañando al país

las hijas de hugo chávez y otros familiares de dirigentes del país

a la hija mayor de hugo chávez maría gabriela chávez se le estima una fortuna de cuatro mil trescientos millónes de dólares

ninguna profesión salvo la ser embajadora alterna

y los hijos hijastros perdón de nicolás maduro

saltaron hace poco a los titulares de los periódicos de madrid porque en dieciocho

el equivalente del sueldo medio mensual de dos mil venezolanos pues si esto es la república bolivariana que quiere nicolás maduro pues apaga y vámonos y sobre todo pobre pobre simón bolívar venezuelak ezin duela jarraitu eta lehen bai lehen

atzokoa da los asalariados vascos pierden quinientos sesenta y seis euros de poder de compra al año es solo una de las múltiples informaciones en ese sentido del goteo de informaciones que estamos recibiendo en el sentido de decir que los trabajadores vascos se empobrecen que sus salarios pierden poder adquisitivo

al tres por ciento los salarios no solo no crecen sino que no recuperan lo perdido en años anteriores

no compensan el efecto de la inflación behin behineko lana gurean ere

reflexiones todos estos avances en la capacidad

en un nuevo estatus político que diera la capacidad a la ciudadanía de este país

en el ámbito de las relaciones laborales para decidir en favor de la mayoría pero a corto plazo entendemos que hay otros desafíos y otras cuestiones a las que también

creo que debería ser la que hoy el grupo de euskal herria bildu propone proponemos

la reforma laboral proponemos pedir su derogación proponemos concretar cuáles son esos aspectos negativos de la reforma laboral y proponemos que

qué decisión tomar al respecto no es la primera vez que hablamos de la reforma laboral en esta cámara la última vez que se llegó a un acuerdo al respecto fue precisamente a instancias del grupo de euskal herria bildu

a la cámara esta reflexión y volver a tomar la iniciativa por cuatro razones fundamentalmente la primera y la más evidente pedimos que se derogaran

y esos aspectos no se han derogado como ya hemos dicho más de una vez los acuerdos son instrumentos para conseguir cosas y a pesar de tener ese acuerdo

de la reforma laboral que perjudican los intereses de los trabajadores y trabajadoras y desequilibran las relaciones laborales otro aspecto fundamental

por tanto vuelve a ser pertinente como hemos hecho en otras ocasiones reiterar

de gobierno la tercera razón para traer esta cuestión aquí es que estamos a tiempo y estamos participando de un debate real que se está produciendo se lleva produciendo en los últimos meses evidentemente cuando trajimos esta iniciativa no sabíamos que este gobierno iba a estar en estos momentos

legislatura pero todavía estamos a tiempo porque nos consta que en otros ámbitos importantes también del sector de la socioeconomía

mediante decretos y decisiones del gobierno y por tanto estamos a tiempo y una última cuestión que queríamos concretar hoy

de la reforma laboral que consideramos lesivos porque es verdad que se hacía una denuncia genérica y se pedía la derogación genérica de esos aspectos de la reforma laboral que han desequilibrado las relaciones pero no se hacía una mención específica a cuáles eran y pensábamos

el rechazo al fin de la ultraactividad a la centralización de la negociación colectiva a las medidas que han impulsado la precariedad

portavoces del resto de grupos les consta que hemos intentado llegar a un acuerdo que hemos mantenido un diálogo pero

una oferta de transacción que creo que era en términos políticos perfectamente asumible yo no sé

pero en todo caso a mí lo que me da la impresión es que en esta cuestión unos el partido nacionalista vasco ha decidido con la cartera y otros elkarrekin podemos y el partido socialista han decidido con la bandera y me explico el partido nacionalista vasco habla mucho de decidir todo aquí

porque cuando hay ciertas cosas que le gustan pero son impopulares casi es mejor que otro cargue con el marrón de vender la moto ante la opinión pública vasca y así el partido nacionalista vasco se ve descargado de la responsabilidad de defender reformas laborales injustas pero con las que quizás en el fondo

en ese caso han decidido con la cartera y otros yo creo que el partido socialista y elkarrekin podemos han decidido con la bandera

porque piensan que es mejor que se negocie en madrid porque es la centralización y la denuncia de la centralización de las relaciones laborales lo que creo que no les apetecía mucho suscribir

por la correlación de fuerzas tanto en el ámbito sindical como en el ámbito político puede ser mucho más favorable para que nunca se aprueben legislaciones como las que se aprobaron en madrid para defender de una forma más efectivas los derechos de los trabajadores y trabajadoras pues aun así prefieren

porque temen que quizás se produzca un efecto de disgregación si tomamos aquí decisiones sobre este tipo de cosas

decisiones identitarias en ambos casos porque es lo que más caracteriza la identidad de cada uno el nacionalismo centralista en unos casos y la defensa de los intereses o determinados

en el otro pero esto no se acaba aquí tal y como he dicho en anteriores ocasiones volveremos se convocan elecciones se formará un nuevo gobierno y trataremos quizás con más

a la hora de hacer los trabajos previos por lo menos con mucha determinación que se pueda sacar de esta cámara un acuerdo claro y nítido que

para la mayoría trabajadora de este país que defina cuáles son y que sea específico que sea asertivo y que sea capaz de que el gobierno de turno tenga una decisión clara de esta cámara que espero sea correspondiente

que es rechazar la reforma laboral pero no de una forma genérica no de una forma testimonial sino de una forma que permita hacer ese rechazo operativo mediante la derogación de dicha reforma

bai egun on señor casanova aunque entiendo su argumentación

en ningún sitio en españa mi bandera es la tricolor pero

nada relacionado con identitario a la hora de no firmar un acuerdo con ustedes en primer lugar porque una vez que no había acuerdo entre ustedes y pnv y partido socialista ambos grupos

de alguna manera dimos por hecho que cada uno veníamos con nuestra iniciativa de hecho ayer

que la propuesta de transacción que había hecho al pnv y al partido socialista yo la veía como buen punto de encuentro

alguna cosita más respecto al tema de las prioridades aplicativas de los convenios

cierta discrepancia que no es una discrepancia total con el tema de la centralización pero cierta discrepancia y hubiéramos podido llegar a un acuerdo sin ningún problema sin ningún problema en base a esa iniciativa que usted me mandó ayer por whatsapp pero cuando ya habíamos dado por hecho que

no me mueve ninguna bandera y en cualquier caso cuando

entendemos que pueden ser positivos en un ámbito estatal no lo hacemos por una cuestión identitaria lo hacemos por una cuestión de que pensamos que determinadas cosas

nosotros entendemos que es un estado plurinacional y donde determinadas cosas si este estado fuese además

como existen estados en el mundo determinadas cuestiones se pueden decidir de manera federal o confederal con la participación de todas y de las diferentes partes pero no era esa la cuestión y nosotros sí reconocemos

la oportunidad de volver a venir con esta cuestión que usted

desde luego se la reconocemos porque efectivamente como ha dicho usted aquello que acordaron en esta cámara que nosotros nos abstuvimos

insuficiente pues efectivamente de aquello no se ha conseguido absolutamente nada en estos momentos y por lo tanto

que ustedes traigan el debate de la crítica a las reformas laborales y de que este parlamento rechace las reformas laborales y porque además efectivamente tenemos un gobierno aunque ya le queda poquito tiempo diferente al que había en aquel momento yo no me voy a extender

en las consecuencias negativas que han traído las reformas laborales comparto

lo que quien nos trae hoy la iniciativa ha expuesto anteriormente comparto las consecuencias absolutamente

y todas las que se han venido haciendo por parte también del partido socialista desde el año dos mil diez en adelante consecuencias absolutamente negativas que de manera muy resumida

donde las condiciones laborales y también de vida de la clase trabajadora que es la mayoría del país

se han degradado y están en una situación mucho peor que antes de todas estas reformas que se han venido haciendo

ocasiones se hacían con objetivos concretos yo creo

que hemos conocido en esta última década desde dos mil diez en adelante

eficaces creo que en esto es en lo único que voy a coincidir con el partido popular aunque por diferentes motivos

eficaces porque han conseguido aquellos objetivos para los que nacieron que era degradar las condiciones en el conjunto del país y en el conjunto del estado y poner

situación muy complicada es decir quitarles las herramientas que tenían las y los trabajadores para defender sus derechos y para conquistar nuevos derechos y en ese sentido sí las reformas

eficaces porque eso es lo que han conseguido un nuevo escenario hoy en día las condiciones laborales y de vida de las y los trabajadores son muchísimo

diez años y los sindicatos tienen las herramientas mucho más degradadas para poder hacer su labor y para poder defender

de trabajo por eso nosotros también pensamos que hoy tocaría en este caso si nos vamos a volver a pronunciar contra las reformas laborales tocaría concretar y lo que creo que hoy va a salir o al menos la enmienda que presenta pnv y partido socialista creemos que no concreta nada

efectivamente nosotros estamos de acuerdo y dice que se tienen que hacer los cambios necesarios para acabar con las consecuencias negativas de aquellas reformas pero eso es muy ambiguo

interpretará que hay que hacer unas cosas u otras por eso nosotros en nuestra enmienda detallamos al menos las cuestiones más importantes que nos parece que hay

como son la recuperación de la ultraactividad de los convenios colectivos no me voy a extender pero esa es una herramienta fundamental para las y los trabajadores volver a hacer que la prevalencia de los convenios sectoriales sea la fundamental y eso además

de la centralización de los convenios en el conjunto del estado y por supuesto acabar con todas las medidas que han favorecido la unilateralidad

de las empresas en las tomas de decisiones modificación de condiciones de trabajo despidos etcétera donde antes había que negociar ahora hay que informar

en estos ocho meses de gobierno del partido socialista de gobierno de pedro sánchez y no se han hecho y se han convocado elecciones

porque ahora parece decir la ministra que tal vez nos encontremos mañana con algunos decretos que han hecho estos ocho meses para tener que venir ahora corriendo en el tiempo de descuento a sacar decretos

deberían haber trabajado para poder revertir esas cuestiones negativas de la reforma laboral porque el partido socialista primero cuando estaba en la oposición dijo que había que revocar la reforma laboral del partido popular

dijo que había cuestiones de la propia reforma laboral que tal vez no se tenían que haber llevado a cabo pero luego ni la del psoe

después eran las cuestiones más regresivas solo las más regresivas de la reforma del partido popular muy bien de acuerdo y a la coalición unidos podemos y elkarrekin podemos en euskadi ahí

porque sabemos que aunque insuficiente es necesario revertir esas cuestiones más regresivas de las reformas del partido popular

no se ha hecho nada llegamos a un acuerdo en el acuerdo de presupuestos generales del estado

se decía explícitamente revocar alguna de estas cuestiones y se decían cuáles antes de finalizar el año dos mil dieciocho no se ha hecho

con qué decreto se va a encontrar mañana desde luego esos decretos que pueda sacar el señor pedro sánchez a modo de campaña electoral que luego nos acusan a nosotros de utilizar las tribunas para hacer campaña

con nadie con el grupo unidos podemos desde luego hasta ayer no los estaba negociando

el martes el ministerio y anularon

que los sindicatos que se han estado movilizando fuertemente este mes y que le han dicho al gobierno no te puedes ir sin tocar las reformas laborales son

junto con la oportunidad de mensaje electoral que le puedan hacer mover al señor pedro sánchez en el tiempo de descuento meterle mano a la reforma laboral desde luego si lo hace nosotros estaremos ahí pero pensamos

no ha cumplido no ha cumplido el acuerdo que tenía con nosotros no ha cumplido la palabra que tenía con los sindicatos

que derogaría la reforma laboral y ha tenido ocho meses para meterle mano lo ha hecho por lo tanto nosotros hoy vamos a mantener nuestra enmienda a la totalidad porque efectivamente pensamos que es oportuno que este parlamento vuelva a rechazar las reformas laborales y también porque pensamos ya que lo hacemos tenemos que hacerlo diciendo las cuestiones más importantes que hay que quitar que hay que tocar de esas reformas laborales

la contrarreforma laboral que es lo que lleva necesitando el estatuto de los trabajadores desde hace muchos años porque el noventa por ciento de las veces que ha sido reformulado ha sido en contra de las y los

a ver si no va a estar de acuerdo con que aunque sea en tiempo de descuento haya decretos

pero le voy a recomendar antes de que vuelva a intervenir en el segundo turno porque le daba tiempo busque usted en google las declaraciones que ha hecho el señor unai sordo con respecto

pregúntese usted lo de las reuniones de la mesa de diálogo social que son por cierto la base para poder llevar también una reforma legislativa en materia laboral en el estado es que esto no es una cosa que decide uno o dos sabe que es un tripartido sabe lo que es la negociación tripartita verdad la sabe

señor casanova cuando leí la justificación de su enmienda

dije pues algo no cuadra aquí hay algo raro entre la justificación y esto que pone aquí abajo de enero de dos mil diecinueve dice usted en la motivación

han acabado con el equilibrio de las relaciones laborales que los trabajadores han visto reducida su capacidad de negociar sus condiciones laborales me paré en ese momento en ese punto como aquí ha hecho usted y pensé pero si esto mismo ya se lo dijo la consejera de trabajo y justicia la señora san josé que le voy a citar textual dice se han adoptado decisiones erróneas en el ámbito estatal y europeo

por los recortes de derechos y esto ha afectado directamente al empleo los salarios y al núcleo básico de la negociación colectiva señor casanova que le estoy hablando del año dos mil diecisiete

sea demasiado tiempo para que esto sea el porqué de su iniciativa máxime si tal y como usted y yo

sabe en el dos mil diecisiete debatimos sobre la situación de la negociación colectiva y alcanzamos un acuerdo un valioso acuerdo desde mi punto de vista entre nuestros grupos entre euskal herria bildu entre el partido socialista el grupo socialista y el grupo nacionalista vasco

iniciativa pero hete aquí que a pesar del acuerdo adoptado

y la verdad no es que sea la primera vez que nos lo propone porque también lo hizo usted en diciembre de dos mil diecisiete a tan solo siete meses de haber aprobado aquel acuerdo

pero lo que nos parece peregrino sinceramente muy peregrino es que

se pretenda justificar la adopción de un nuevo acuerdo porque según usted y lo ha puesto

se ha producido un cambio de gobierno en españa a consecuencia de una moción de censura

titular de ayer de ayer el titular es de ayer cambio de gobierno por moción de censura

y que ya está abierto en madrid decía en el congreso de los diputados el debate en torno a la modificación de la reforma laboral todo esto justifica su propuesta hombre

en fin así que me tiene usted que comprender cuando le digo que ahí empecé a sospechar pues que algún interés debe de haber y que a mí se me estaba escapando para que en base a estos sucedidos que usted me estaba justificando

compartimos el análisis de la situación de la negociación colectiva que ha producido es verdad un cambio sustancial en el modelo de relaciones laborales que hasta este momento teníamos un diagnóstico que usted y yo sabemos que lo compartimos también con los sindicados

de distribución de renta y de poder en las relaciones socio laborales es verdad

pues lo que han hecho ha sido romper el equilibrio negociador y han dado un mayor poder al empresario que ya era de por sí la parte más fuerte de la relación laboral yo se lo he dicho

la reforma laboral dio la vuelta como un calcetín a nuestro mercado laboral lo desregularizó

la ley del más fuerte desequilibrando las relaciones en favor de las patronales un poder además que los empresarios

a dudas para dificultar o incluso impedir la consecución de nuevos acuerdos pero también les repito como lo he hecho en las demás ocasiones en las que se ha traído este debate

unidad de acción sindical y dos un cambio legislativo que revierta la situación restablezca el equilibrio es decir que se revierta la reforma laboral lo primero

le compete a los sindicatos y ya se lo pedimos usted y yo en aquel acuerdo ya se lo pedimos lo segundo les corresponde a nuestros compañeros en el congreso de los diputados y también se lo hemos pedido en aquel acuerdo usted y yo también se lo pedimos es más usted y yo sabemos o deberíamos de saberlo que en eso es en lo que han estado ocupados estos últimos meses y sabe que a pesar de los escasísimos días

el gobierno socialista de pedro sánchez ha anunciado que va a utilizar la vía del decreto para aprobar medidas en este tema en concreto cuatro la implantación en las empresas de un registro de la jornada laboral de sus trabajadores

la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa y la modificación de las subcontratas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores

pero yo también sé y espero que ustedes también que estas modificaciones van en el sentido correcto por eso mi susto cuando el señor jon hernández criticaba un poco que se pudiera utilizar esta vía por tanto

en varias ocasiones es devaluar los acuerdos que tiene este parlamento

trayendo la renovación de acuerdos que ya existen que ya están adoptados que se están teniendo en cuenta por nuestros compañeros en el congreso de los diputados porque en eso señor casanova no nos va a encontrar no va a encontrar al partido socialista ahora bien

en lo que ha aparecido a los diez minutos de empezar usted su intervención en los puntos tres cuatro y cinco y usted ya sabe a lo que me refiero pues a esa línea argumental que es para ustedes prioritaria

y que se sostiene en una falacia que ustedes también nos repiten una y otra vez y que pasa así como muy básicamente por el tema o el lema de la independencia de euskadi sería la panacea todo lo arreglaría

pues usted sabe perfectamente que no se tiene que esforzar mucho en convencerme de ello porque no lo va a conseguir nunca por eso no ha sido posible llegar a una transaccional con usted

o cuando hemos estado en este tema sabíamos dónde podía estar el escoyo si realmente el objetivo era el otro pues eso lo podíamos dejar señor casanova usted sabe que los socialistas yo se lo he dicho y se lo pienso repetir no me voy a cansar de ello

herramientas eficaces para desarrollar un marco de relaciones laborales propio

herramientas que sí son eficaces pero para que sean útiles tienen que ser utilizadas tienen que ser usadas y en eso es en lo que nos empeñamos los socialistas todos los días en facilitar lugares de encuentro y de diálogo permanente en favorecer que se abran vías de concertación para lograr el objetivo de que en euskadi todo trabajador y toda trabajadora

que es la que le daría un convenio colectivo firmado y aplicable en esta comunidad autónoma usted y yo sabemos señor casanova que desde el año dos mil diecisiete desde enero

el famoso acuerdo de estructura que se firmó por todos los sindicatos y la patronal

que está tardando en llenarse de contenido pero usted y yo sabemos que eso no lo podemos hacer nosotros nosotros no podemos llenar de contenido ese acuerdo de estructura

que son los sindicatos y la patronal eskerrik asko castelo

sailburuak legebiltzarkideok eguerdi on denoi revisaba el otro día el video del debate que sobre esta cuestión manteníamos en diciembre de dos mil diecisiete después del debate de mayo del dos mil diecisiete

tono que yo mismo utilizaba al dirigirme a usted señor casanova

el parlamento insta al propio parlamento y a sus grupos parlamentarios a que respeten los acuerdos adoptados y no estén continuamente planteando los mismos debates

rebus sic stantibus por eso hoy ya mi tono no es aquel

con más ánimo hoy es otro el tono nos plantea debate usted otra vez en relación a esta iniciativa

otra vez en relación a esta iniciativa a la que le ha dado el título de anulación de las reformas laborales que han perjudicado los derechos de los trabajadores y trabajadoras vascas

le pido disculpas porque me voy a centrar más en la cuestión planteada por el señor casanova y también

que no está en el reglamente pero una enmienda de remisión porque es concreta la nuestra se concreta se concreta en los tres puntos

para cimentar su iniciativa señor casanova realiza una análisis en su justificación y quiero reconocer basta que le voy a decir una cosa positiva no me está oyendo quiero reconocer

como he comentado un poco recurrente puedo constatar que en gran medida coincido con usted en gran medida no en todo y como dice ese aforismo anglosajón el diablo se esconde en los detalles

en base al esquema de su justificación quiero argumentar mi posición en el ordenamiento jurídico del estado se ha introducido multitud de reformas laborales desde mil novecientos setenta y siete en octubre luego en diciembre del setenta y nueve enero del ochenta junio del ochenta y uno febrero del ochenta y tres

en total diecinueve una reforma laboral cada dos años y medio hasta hoy nosotros sobre todas y cada una de ellas hemos tenido

ha habido alguna pocas como la de la honrosa excepción de mil novecientos ochenta

polémicas o discutibles en cualquier caso en cualquier caso en todas ellas hemos intentando influir con mayor o menos éxito pero siempre con la misma brújula la realidad laboral vasca

usted centra en su análisis en las reformas laborales del diez diez once la del gobierno de rodríguez zapatero y la del doce la del gobierno de rajoy también voy a centrarme en ellas

diferencia entre algo que no es bueno con algo que es muy malo son también diferentes en la forma en los contenidos en los impactos lesivos nuestra posición ante la reforma laboral del diez once

después de estudiarlas hoy seguramente presentaríamos una batería similar con esas enmiendas tratamos de adaptar la reforma a las características específicas de la economía vasca

en la que el valor añadido que aportan sus trabajadores y trabajadoras tiene un importante peso respondieron también

cada vez más cambiante que tiene que afrontar permanentemente nuevos retos y que descansa sobre una singularidad ligada

enmiendas que son una apuesta clara por reforzar los derechos laborales aquellos citando a nuestro diputado en aquel debate se ha podido evitar la regularización absoluta que suponía la liquidación de los fundamentos axiológicos de los fundamentos

de este sector del ordenamiento jurídico y se ha corregido porque ha habido cierto parlamentarismo cierto

del desempleo es dudoso sin la concertación sin el apoyo y la complicidad de los interlocutores sociales

nuestra posición ante la reforma laboral del dos mil doce consideramos que pervirtió la negociación colectiva como clave de bóveda la configuración de las relaciones laborales

señor casanova lo décimos así deslizando a la representación empresarial facultades de negociación e imposición que desequilibraron los sistemas de convención colectiva concentrándose fundamentalmente en la posibilidad del empresario para inaplicar o descolgar del convenio condiciones de trabajo muy relevantes jornada horario retribución mejoras voluntarias

otra facultad que desequilibra la igualdad de las partes negociadoras

posibilidad que permite modificar a peor los derechos de los trabajadores a nuestro juicio

que debe tener un carácter bilateral en un sector del ordenamiento jurídico con un carácter unilateral consideramos también que debilitaba claramente el artículo treinta y siete

siete de la propia constitución el ocho de marzo del dos mil doce nuestro grupo parlamentario

hoy tenemos la misma posición que teníamos respecto a estas dos reformas laborales la misma por lo que el objeto que persigue su iniciativa anularlas o más concretamente instar

pero aquel acuerdo del veinticinco de mayo va mucho más allá que lo que hoy usted plantea no lo entiendo

pero con el objetivo de establecer un modelo de relaciones laborales que garantice el equilibrio

creo que aquel acuerdo es mucho más ambicioso que su anular de hoy

tachando con el tipex las normas que han pervertido el ámbito del derecho laboral no se multiplique por cero hay que cubrir la laguna

decía anteriormente que el diablo se esconde en los detalles me gustaría volver a analizar algunos detalles

nos describe en su justificación una realidad la realidad social vasca

por desgracia que hecha reformas han logrado sus objetivos los detalles yo le diría mi realidad

dichas reformas por desgracias dichas reformas han logrado en parte sus objetivos en parte

aparece una realidad nueva normativa nos enfrentamos a riesgos

priorización de los convenios de empresa de acuerdo pero le pregunto

automáticamente se convirtieron se han convertido en materialización real usted dice que sí yo digo en parte

y hay que atender algunos detalles y yo hablaba antes de posibilidad posibilidad de la empresa de hacer esto posibilidad de la empresa la empresa vasca se ha comportado así

no se ha comportado así con carácter general detalles otros detalles el riesgo de caer en convenios de empresa decía usted el riesgo de

y autonómicos detalles pero hay fotos como una que tengo yo aquí que dice hombre cómo se han comportado los sindicatos

antes y después de la reforma atendiendo a su representatividad y a su tasa de cobertura tasa de cobertura que es la protección que dan con carácter general

igual alguien nos tendría que explicar no pero usted no ve la foto pero sabe de lo que le estoy hablando perfectamente igual

los detalles el diablo está en los detalles alguien debería explicarla hemos presentado enmienda a diferencia de lo que ocurrió en diciembre a su iniciativa y vamos en contra de su texto

una distorsión de un buen acuerdo y una devaluación de la voluntad negociadora de esta cámara con esta postura considero más vivo que nunca el acuerdo del veinticinco

estable y de calidad y que impulsa la negociación colectiva desde el pacto del diecisiete de enero al que hacía referencia la señora castelo y desde la prioridad del ámbito vasco de negociación

cincuenta y cinco apoyos aquí aquel día cincuenta y cinco apoyos hoy con un planteamiento mucho menos ambicioso que aquel dieciocho

realmente me parece un poco sin más nosotros volvemos a revindicar aquel texto que por cierto como decía lleva su firma

aquel texto a través del cual conseguimos

a usted le vuelvo a citar a usted llegar a un buen acuerdo y mandar un mensaje positivo a toda la oposición vasca eskerrik asko

muchas gracias señora presidenta miembros del gobierno buenos días otra vez señor casanova señor hernández

tristemente además tristemente porque a ustedes se les llena la boca cuando hablamos de materias laborales

los acuerdos sociales deben estar siempre respaldados por las mayorías políticas los acuerdos sociales deben estar respaldados por las mayorías sindicales han subido los dos a esta tribuna a pedir que el gobierno de españa

directamente es decir están pidiendo a un gobierno que está en funciones que le quedan dos tres días

derogando una reforma laboral e imponiendo algo nuevo que no ha sido pactado con ningún partido político

y que no cuenta con el respaldo social de los representantes de los trabajadores

les dieron plantón esta misma semana para no poder negociar absolutamente nada ni dar su opinión sobre esas posibles

vía decreto va a aprobar el consejo de ministros todos recordamos y oímos al presidente del gobierno en su otra faceta vital antes de que fuera presidente del gobierno diciendo que lo primero que iba a

era la reforma laboral porque era uno de los grandes males que tenía este país y en ese sentido se le exhortó aquí en mayo de dos mil diecisiete en ese

hacer una contra reforma laboral o una nueva legislación laboral aplicable

las anteriores lo cierto es que ustedes todos ustedes me refiero a todos sus grupos políticos en madrid apoyaron un cambio de gobierno y desde que

no se han acordado de promover esa reforma legal todos en conjunto

solo para ver cómo se debatía me refiero a un concreto texto legal

que se puede debatir diciendo habría que cambiar esto no somos los competentes tienen ustedes las mayorías y no han hecho nada y hoy vuelven a subir a la tribuna para decir que tendríamos que cambiar esto y tenemos que hacerlo y se lo encargamos a un gobierno

en cuestión de días soslayando por completo el diálogo con los representantes de los empresarios con los representantes de los trabajadores el diálogo

sinceramente un completo dislate me parece una locura

de la necesidad de tener un marco propio de relaciones laborales bien

de continuo y con el que yo no he estoy de acuerdo y se lo he explicado muchas veces he intentado explicarle nuestro punto de vista yo no creo que en este momento las decisiones del marco de relaciones laborales deban tomarse aquí porque mire los representantes de los trabajadores

dicen que no son legítimos que no están elegidos y que ellos no se sientan a negociar nada con esos representantes de los trabajadores los representantes perdón de los empresarios los representantes de los trabajadores critican ferozmente al gobierno porque no cuenta con ellos para tomar decisiones

estar todos los miembros de la mesa de diálogo social una mesa que está medio vacía y que apenas funciona precisamente porque esos representantes de los trabajadores

los sindicatos quieren hacer política y no quieren defender los derechos de los trabajadores con lo cual nos encontramos con una bomba de relojería firmamos a traer aquí todos la capacidad normativa para ese diálogo social para que unos no se reconozcan a otras y no lleguen a absolutamente

yo en esa situación señor casanova siempre le he dicho que entiendo que no tenemos que reducir a esta imposibilidad de acuerdo

que gracias a esta reforma laboral han encontrado un puesto de trabajo mire se destruyeron

de empleos gran parte de esos empleos de han recuperado señor hernández usted dice que esta

si hay algo que degrada realmente la condición de un trabajador es

la propia calificación de trabajador es ser un desempleado eso es lo peor que le puede ocurrir a un trabajador querer trabajar y no poder hacerlo parte de esos tres coma cinco millónes de empleos que se perdieron en aquel momento ya se han recuperado hay más contratos indefinidos que entonces hoy la temporalidad que es muy alta que yo no le digo que no se ha reducido respecto a esos datos del dos mil once

el empleo de las mujeres ha crecido a niveles que nunca habíamos tenido los niveles de afiliación a la seguridad social están creciendo a un buen ritmo hasta que ha llegado el nuevo gobierno socialista y los datos de empleo están ahí ya los hemos visto ya los hemos debatido vamos a hablar de ellos

y todos nos hemos llevado las manos a la cabeza porque esos datos no son positivos señor hernández luego ese cambio no ha sido positivo para los trabajadores desde mi punto de vista y le hablo de datos exclusivamente de datos en dos mil diecisiete el señor casanova me decía que si se estaba creando empleo si

se reducía no era por las políticas llevadas a cabo en materia laboral por el partido popular sino por la marcha de la economía europea y es cierto

los salarios tuvieron que bajar pero los salarios se empezaban a recuperar la realidad señor casanova y el tiempo

cuando ha habido un gobierno diferente en españa el ritmo de crecimiento ha descendido la creación de empleo ha descendido y la precariedad laboral ha subido esa es la realidad y en europa no ha habido cambios fundamentales los cambios fundamentales ha habido en el congreso de los diputados en madrid con una moción de censura que todos sus grupos impulsaron

a menores de momento a menores cotas de crecimiento por eso insisto en que me parece un auténtico dislate exhortar a un gobierno en funciones

reforma laboral cuando no va a poder debatirse en el congreso de los diputados y no va a poder acordarse con los representantes sociales que es donde deben llevarse a cabo
todas estas negociaciones por ese motivo votaremos en contra de sus iniciativas gracias eskerrik asko ruiz de arbulo jauna

el parlamento vasco con los votos entre otros de su grupo parlamentario pide al gobierno del estado que presente en el plazo de seis meses un calendario para culminar las transferencias pendientes del estatuto junio

el parlamento vasco con los votos de su grupo entre otros pide al gobierno central

qué ha cambiado que ha cambiado el gobierno efectivamente una cosa es pedir una cosa a un gobierno y otra es que haya un gobierno distinto y se vuelva a pedir la misma cosa a un gobierno distinto

que el primer gobierno dio la callada por respuesta y el segundo activó un proceso

dio acuse de recibo y empezó a moverse por tanto sí tiene sentido pedir lo mismo si han cambiado las circunstancias y usted y su grupo han sido participes precisamente

señora castelo hoy usted estamos hablando de explotación y precariedad es un ejemplo su grupo la está explotando un poquitín la está exprimiendo bien

cartas en el asunto pero los acuerdos

los acuerdos de este parlamento desde mi humilde punto de vista lo que tienen es un objetivo

es para conseguir lo que está reflejado en ese acuerdo es el mismo debate que hemos tenido anteriormente eso no significa llegar a un acuerdo y decir qué contentos estamos del acuerdo tan chulo que nos ha quedado

y esa reforma no se ha derogado lo que tenemos es que valorar es cómo dar un paso más

los acuerdos son un mecanismo para transformar las cosas y si un acuerdo no ha cumplido su función lógicamente hay que buscar renovar ese acuerdo impulsar ese acuerdo modificar ese acuerdo

con usted sobre la derogación de la reforma laboral lo que quiero es que se derogue la reforma laboral pero no es que lo quiero yo es que su propio partido dice que lo quiere pero no es que lo diga ahora

lo dijera el actual presidente en su anterior vida es que en el dos mil once

el gobierno aprueba una reforma laboral que promete derogar en dos mil once y decía el propio periodista decía escaso entusiasmo lógicamente claro si el día que estas aprobando ya dices que cuando cambie la situación lo vas a derogar pero el problema es que no se ha derogado

en la propuesta de euskal herria bildu y gracias a ese análisis

muy bien se lo podría haber dicho yo creo que no había ninguna duda al respecto pero la propuesta de hoy

del pp el otro día que decía que una transferencia más y se aumenta la desigualdad entre los españoles

en otros espacios no era el debate de hoy lo que hoy le estoy tratando de plantear es que tal y como denunciaba su situación de precariedad en el grupo parlamentario

mayoría a la que usted ha hecho referencia la mayoría de la moción de censura esa moción que se sostiene justo justo y por los pelos y que ya veremos qué pasa después de las elecciones y esa mayoría que exista esa mayoría en madrid o que exista otra mayoría lo que va a significar es que los ciudadanos vascos de esta país tengamos o más o menos derechos en el ámbito laboral porque aquí los derechos mientras sigamos dependiendo del estado español son derechos de quita y pon según quién esté en el gobierno los quita o los pone aborto ultraactividad

es decir derechos de juguete que un día valen y otro día no valen y aquí en esta cámara y eso es a lo que me estoy refiriendo

la mayoría de la moción de censura no tiene una mayoría precaria tiene una mayoría del noventa por ciento

para tirar cohetes ni para hacer la revolución pero evidentemente respecto a la sensibilidad con los derechos laborales aquí hay un marco estructuralmente mucho más favorable que en el estado español para legislar a favor

y si ustedes se niegan a eso que no es la independencia sino decidir aquí para tener un marco de decisión más favorable a los derechos de los trabajadores y trabajadoras no lo están haciendo porque estén pensando en esos derechos precisamente sino porque están pensando en conservar la unidad del estado y bueno el capítulo de la negociación siempre es un poco aburrido si el problema ha sido un malentendido al señor

que di por hecho que ustedes en el ámbito de la centralización no se querían meter y para mí era una cuestión fundamental si ha sido un malentendido la próxima vez no habrá ese malentendido ya le he dicho que no voy hacer

trataré de hacerlo mejor y de llegar también a un acuerdo pero me daba la impresión de que para ustedes era una línea roja y que por tanto ahí no había ninguna posibilidad por tanto volvemos a pedir es un debate también usted ha descubierto que el debate está en marcha no yo en enero

formara parte activa de este debate que está en curso en estos mismos momentos y cuando el gobierno mañana se siente a analizar esta cuestión

dentro del expediente tuviera aunque solo sea con carácter simbólico un llamamiento de la mayoría de esta cámara que le dijera oiga tienen ustedes unos compromisos este país euskal herria el país vasco o esta parte de euskal herria les pide

esto esto esto y esto y esa era la aportación que queríamos hacer precisamente el hecho que el debate esté en curso

todavía más oportuna desgraciadamente ustedes han preferido no comprometerse a pedir nada concreto

sí desde luego a nosotros claro que nos parecía nos parecía importante que haya que concretar yo estoy de acuerdo con esa última parte que dice el señor casanova

no solo que queremos derogar la reforma laboral sino sobre todo señalar qué es lo que hay que cambiar de la reforma laboral o mejor dicho

del estatuto de los trabajadores y por eso sí nos parece que la enmienda que presenta pnv y partido socialista es inconcreta

aquel acuerdo anterior que tiene tres puntos sobre la reforma laboral a la reforma laboral

y lo que dice es exactamente lo mismo que dicen en su enmienda de hoy

no a la reforma laboral y vayamos a eliminar la parte más lesiva de la reforma laboral

me parece bien muy respetable a mí me parece que eso no es concreción nosotros hemos presentado una iniciativa donde décimos qué cuestiones concretas

porque yo derogaría toda la reforma laboral qué cuestiones son las que nos parecen fundamentales que se tienen que cambiar y sí

sí nosotros no somos los únicos también lo han hecho los sindicatos eso es lo que aparece en google cuando busca unai sordo comisiones obreras que usted me lo ha recomendado

que sí que lo haga que lo haga ahora porque no lo ha hecho antes y ya solo le queda hacerlo ahora vía decreto y porque era una promesa y porque él lo prometió

prometió que derogaría la reforma laboral del partido popular y no y no lo ha hecho no no se escuden ustedes en las negociaciones y en las mesas tripartito no lo ha hecho porque tienen miedo

no lo han hecho porque la patronal presionó desde el minuto cero porque es la misma patronal que cuando quisieron poner en marcha las reformas laborales

que ya estaba bien de ganar tanto que nos teníamos que acostumbrar a ganar menos y a trabajar más era la misma patronal que nos decía

renunciar a él aunque fuera en laponia esa misma es la que ha presionado para que no se hicieran cambios en el marco laboral cuando el partido socialista llegó al gobierno porque yo no comparto lo que ha dicho usted señor ruiz de

ejerciendo labores de parlamentario no es perder el puesto de trabajo

las trabajadoras y los trabajadores tenemos dignidad y yo prefiero perder el puesto de trabajo a tener un puesto de trabajo tan mísero que sus condiciones sean indignas y estoy convencido

aunque necesitemos ese puesto de trabajo para vivir tenemos dignidad

estoy convencido por eso no es lo peor pero es que no es una disyuntiva no se trata como plantea el partido popular de que las reformas laborales sean para conseguir acabar con el desempleo no hay porqué elegir entre tasas bajas

y condiciones buenas de trabajo y eso es lo que plantean las reformas laborales de los últimos años cambian puestos de trabajos precarios

y lo hemos dicho nosotros más de una vez así es más o menos fácil cuando hay coyunturas económicas favorables crear sí puestos de trabajo porque hay una rotación constante yo puedo firmar catorce quince contratos en un año o más se han creado catorce quince puestos de trabajo

por lo tanto nuestro grupo nos parece que si es en el cuento en el tiempo de descuento y unos meros cambios cosméticos estoy seguro que el gobierno que sale encontrará el apoyo de mis compañeras y compañeros en el grupo confederal de unidos podemos mañana no sé qué es lo que nos vamos a encontrar pero también

le temblaron las piernas cuando firmamos un acuerdo relacionado con los presupuestos generales del estado y le han temblado ahora las piernas tiene la presión de los sindicatos detrás y unas elecciones en

y por lo tanto por eso el partido socialista mañana sacará esa serie de decretos que no sabemos exactamente cuáles van a ser la señora castelo desde luego tiene más información que yo

con los sindicatos tan importante que es la mesa tripartita tampoco está hablando y por eso le están pidiendo que haga algo antes de irse eskerrik asko hernández jauna

es una cuestión yo no tengo más información señor

pero sí tengo mucha más confianza que ustedes en el gobierno socialista de pedro sánchez muchísima más confianza

de que no será un cambio cosmético o llámele usted cambio cosmético pero si se vuelve a recuperar la ultraactividad de los convenios a mí ya me parecerá suficiente como mínimo

con ese halo independentista poniéndolo por delante a lo que son los intereses sociales de las personas porque yo no voy por la unidad de españa usted ahí está

yo vengo en defensa de la igualdad de todos

creo que tiene que tener la misma igualdad de derechos y la misma protección

creo que el ámbito de decisión en el congreso de los diputados es correcto para ello y la verdad no se ha soslayado en ningún momento

en la mesa de diálogo social es un diálogo tripartito en el que es verdad hay dificultades

en ello se está ahora también es cierto que intentar ustedes y yo que somos parlamentarios decir que la reforma del estatuto de los trabajadores que es una reforma

se puede realizar de una forma consensuada y con diálogo tripartito en ocho meses de legislatura pues hombre nos lo tendríamos hacer mirar nosotros porque con normas bastante menos de envergadura como puede ser las ley del sector público o la ley de transparencia

entonces en fin ya ahí estamos implicados directamente por lo tanto

y si hay algo que a mí me parece un dislate

pues fue precisamente las reformas laborales que hizo el partido popular pero el más dislate es todavía que ustedes sean capaces de baja a esta tribuna y decir

puestos de trabajo desde aquella reforma ustedes no han creado

para saber en qué condiciones y con qué calidad de empleo

de trabajar ocho meses y cómo con aquellas herramientas que ustedes le dieron a la patronal

que seguramente usted y yo no estaríamos dispuestos eskerrik asko castelo

eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakari hay algo muy positivo en el debate de hoy y yo pensaba que iba a ser bastante más menos animado por reiterativo

sin embargo en esta se ha animado y eso es tremendamente positivo y me encanta

señor hernández discrepo discrepo cómo que no es concreto y cómo que solo el primer punto hace referencia a la reforma laboral

a la parte general el segundo punto en el cual se recoge acometer en el marco de la negociación colectiva una subida

que era el objeto concreto de aquel debate no es parte de la reforma laboral hombre no es parte de los planteamientos de descuelgue

y el tercer punto el acuerdo interprofesional los planteamientos relacionados

yo de verdad en cualquier caso

lo volverá a traer bien fenomenal de todas maneras yo creo que hay

avanzar en el acuerdo sobre la base de un acuerdo avanzar y avanzar en contenidos y este acuerdo del veinticinco

por qué no sí sobre todo el punto tercero otros también pero sobre todo el punto tercero avanzar en contenidos por qué no utilizamos esta base

y avanzar en aglutinar a otras voluntades

ha hecho hoy no es avanzar porque ha planteado un texto a mi juicio mucho menos ambicioso que este y ha conseguido

no hoy lo hemos visto claramente no voy a analizar mucho más esta cuestión pero

a mí me preocupa porque tengo la sensación de que usted y cuando habla de tiempo

cuando habla de tiempo no se acuerda del tiempo que trascurrió

entre el acuerdo del veinticinco de mayo y una reacción que hubo el treinta de mayo y yo creo que a usted a usted este acuerdo le da un problema en ese sentido en una reacción que hubo el treinta de mayo

y que calificó de irrelevante este acuerdo con lo cual para usted ya este acuerdo ya no es base por eso también me gusta que este acuerdo esté hoy en este debate

porque no es irrelevante no es irrelevante bueno en cualquier caso nosotros seguiremos en nuestra perseverancia seguiremos en nuestra perseverancia lo que le he comentado porque estos partidos se volverán a jugar aquí y en otras cámaras se volverán a jugar y continuaremos en esa perseverancia en el congreso

años y medio por reforma es decir llegarán es posible que llegue

y cuando lleguen o cuando lleguen aquí estaremos en los acuerdos como este y cuando lleguen donde lleguen las reformas
en este momento ahí estaremos a ver si nos vemos allí eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna

gracias señora presidenta señor hernández evidentemente yo no vengo a decir aquí

no eso desde mi grupo lo hemos defendido en muchas ocasiones

la precariedad es mejor ahora a pesar de ser muy elevada antes de la crisis el número de trabajadores indefinidos es superior hoy a los que había en el dos mil siete la temporalidad ha bajado considerablemente desde entonces sí que es cierto que en mitad de la crisis gracias al gobierno socialista hubo un índice de temporalidad mucho menor pero era porque la mayoría de los trabajadores temporales se habían ido a la calle habían perdido su puesto de trabajo

nosotros defendemos que hay que hacer mejoras pero las mejoras hay que hacerlas

debatiéndolo con los agentes sociales y llevándolo al congreso de los diputados y no exhortando hoy a que en el minuto de descuento venga alguien y trasforme el mercado laboral vía y esa intención que tenían todos ustedes cuando votaron este acuerdo aquí en dos mil diecisiete se ha diluido con el tiempo es decir el acuerdo que habían logrado en dos mil diecisiete era un acuerdo contra el gobierno de rajoy y volvieron a acordar ustedes de nuevo para que el señor rajoy

y a partir de ese momento nos olvidamos todos de la reforma laboral todos se han olvidado y nadie ha hecho nada nadie ha registrado una sola iniciativa nadie le ha requerido a ese gobierno que haga algo en el congreso de los diputados

nadie le ha exigido al gobierno que retome esa reforma laboral que pedía a gritos desde la oposición y lo cierto es que ese periodo de gobierno que impulsaron todos ustedes se les ha pasado volando a los miembros del gobierno y como se les ha pasado volando no han tenido tiempo de hacer nada

que ahora lo hagan en el minuto de descuento en el consejo de ministros de mañana una reforma laboral sin contar con los representantes de los trabajadores sin contar con los representantes de los empleadores de los empresarios sin contar con ninguno

políticos presentes en el arco parlamentario más que aquellos que sustentan al gobierno a los que posiblemente ni siquiera les han llamado por eso precisamente nosotros nos mantenemos firmes en la posición que teníamos en dos mil diecisiete y votaremos en contra

hemen egoteagatik hoy traemos una iniciativa que se ha construido a partir del trabajo de las mujeres con diversidad funcional desde distintos ámbitos y organizaciones que llevan ya años elaborando y poniendo en la agenda

todo este tema todo este trabajo acumulado ha estado

para llegar al acuerdo que tienen sobre sus mesas y estarán presentes gracias al esfuerzo de esta casa también en el camino que hoy se abre zorionak y gracias por ser tan generosas en euskadi según el ine en dos mil diecinueve hay ciento ochenta y tres mil quinientos personas con algún tipo de discapacidad

mujeres que como cualquier otra mujer en esta sociedad patriarcal y machista están en una situación de partida de desventaja respecto de los hombres

pero además vivimos en una sociedad que es todavía muy complicada para personas con diversidad funcional así que a esa losa que todas cargamos en nuestra mochila

las hace sujetos doblemente discriminadas pero también doblemente resilientes emakumeok genero

elbarrituek jasaten duten diskriminazioa gehitu behar baitzaio se estima que el cuarenta por ciento de las mujeres con discapacidad sufre o ha sufrido alguna forma de violencia

en estudios realizados en estados unidos por ejemplo las mujeres con discapacidad sufren entre dos y cinco veces más episodios de violencia de género

es intelectual una resolución del año dos mil seis del parlamento europeo habla de un ochenta por ciento de mujeres y niñas con discapacidad que han sufrido o sufren algún tipo

de violencias y discriminaciones por motivos de género y también por parte de las instituciones o de las personas que les brindan cuidados y apoyos que necesitan para desenvolverse en una sociedad que es poco accesible para todas y todos

pero tenemos que reconocer que hay estigmas que acompañan a la discapacidad y que hacen que en ocasiones se vea a estas personas especialmente cuando son mujeres como seres de menor valor

dice que la ausencia de representaciones de su identidad favorece la percepción

soledad arnau habla de mitos asociados a la discapacidad que dan lugar a los abusos y malos tratos a los que las mujeres con discapacidad sufren como pueden ser la deshumanización asociada a limitaciones la mercancía dañada como si el abuso sobre ellas no supusiese una pérdida la insensibilidad al dolor el mito de la amenaza de la discapacidad que puede hacer que lleguen a ser incluso

de la indefensión mitos que como su propio nombre indica no se ajustan a la realidad ni al a verdad pero que trascienden y ensombrecen el día a día de miles de mujeres benetan

oztopatzen dute el informe apoyo psicosocial y prevención de la violencia de género en mujeres con discapacidad del año dos mil doce establece que existen condiciones específicas que propician la violencia machista sobre las mujeres con discapacidad más allá

la imposibilidad de acceder a recursos disponibles para situaciones de violencia de género por no ser estos accesibles o por no ser accesible la información

en discapacidades que afectan a la comunicación la imposibilidad de defenderse físicamente del agresor o el miedo a perder a un compañero maltratador porque de él dependen las actividades para realizar su vida diaria no son pocas las razones desde luego y en ningún caso están justificadas o son por explicarlas menos terribles

al gran trabajo que todas tenemos como sociedad a la necesidad de mayor y mejor sensibilización

pero otras que son las que hoy nos ocupan obedecen a la creación por parte de las instituciones y las políticas públicas de espacios recursos y servicios que no son accesibles es una pena que parezca que a la consejera no le interesa demasiado

son menos visibles o menos conocidas no es falta de voluntad es inercia de no tener en cuenta a lo que no se ve demasiado dicen en el informe

sino de entender cómo se unen los distintos factores para crear esas condiciones en que las mujeres con discapacidad se ven abandonadas o expuestas a situaciones de riesgo o vulnerabilidad

en situación de mayor riesgo y de cómo protegerse o protegerlas es por todo esto por lo que en elkarrekin podemos consideramos indispensable una mirada específica

de factores de exclusión igual que décimos que resulta indispensable poner la perspectiva de género en todo lo que se hace a pesar de la falta de esa mirada en muchas de las políticas públicas actualmente existentes

seguir sin incorporar la accesibilidad como un elemento transversal a todas ellas

el debate de la iniciativa que ponemos sobre la mesa ekimen honen bidez dibertsitate funtzionala duten emakumeak eta neskak

una iniciativa como decía para garantizar que mujeres y niñas con diversidad funcional en euskadi puedan vivir de manera independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida en igualdad de condiciones porque el ejercicio real y efectivo de los derechos la autonomía plena el empoderamiento es de justicia pero es también un factor clave

de las violencias sobre niñas y mujeres una prevención que sin el trabajo y el impulso de los poderes públicos por sí sola nunca lo va a tener vamos a dar luz con este acuerdo y ampliar pretendemos tomando prestadas las palabras de eginaren eginez

poner bajo la luz esta situación porque para quienes la sufren no tiene

hoy se da un paso para ampliar nuestros conocimientos y nuestro trabajo y un pasito para

en elkarrekin podemos consideramos que todas las personas deben de tener acceso a sus derechos y para ello es indispensable que haya conocimiento y que se escuche

es fundamental para ello poner medios herramientas palabras debates en definitiva lo que este en nuestra mano para mover el foco de atención sobre una realidad que no se ve no se quiere ver y no se quiere dejar ver de hecho parece que ni siquiera se quiere escuchar lo que este en nuestra mano para trabajar más y mejor sobre una realidad en la que además de la distancia

sufren mujeres que tienen que sumar a su condición nuevos techos nuevos o dobles techos de cristal suelos doblemente pegajosos que no las dejan desarrollar todo su potencial o todas sus capacidades que no les dejan en definitiva vivir en libertad

porque la percepción del género y la discapacidad como construcciones sociales que son pueden y deben ser modificadas en pro de la igualdad y esa en nuestra opinión es una de las claves para empezar a transformar la situación actual y permitir y fomentar

en igualdad para ello es necesario entre otras cosas que todas las políticas institucionales contemplen el género y la discapacidad de forma transversal que se evalué cómo

baina herritar askok emakumeek kasu ezin dituzte erabili existen herramientas de ámbito europeo y también en euskadi para facilitar e impulsar que las políticas integren esa doble mirada utilicémosla

con el firme propósito de asegurar la presencia y participación de este sector

y no discriminación catorce años después a través del segundo manifiesto se actualiza los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad de la unión europea dos puntos una herramienta para activistas y actores políticos nos interpelan directamente nosotras recogemos el guante

han pasado diez años desde entonces y hay otros ámbitos de la diversidad y otros territorios desde los cuales no hubo oportunidad de aportar en ese momento nosotras consideramos que si se pretende

todas estas herramientas pero también ampliarlas y actualizarlas y en definitiva escuchar a quien sabe a las protagonistas de estas luchas cotidianas e insisto tan

aprender de y con las personas protagonistas para no dejar a nadie fuera y ponernos de una vez en marcha hacia la mejora real hacia una mejora

hechas en el año dos mil ocho de las que se ha implementado entre poco o nada nos habla de prevención de detección de recursos de buenas prácticas de cuestiones

y no es lo único por ejemplo como nos decían ayer cuántos años se lleva insistiendo para que en los casos de violencia se pase el cuestionario iris que permite

las mujeres con discapacidad la herramienta es del año noventa y siete saquen cuentas cuántas veces hemos visto u oído situaciones en el que las mujeres diversas son anuladas o ignoradas como si no fueran sujetos de derecho

porque sus vidas se relegan al cuidado sin respiro sin alternativas sin descanso sin derecho

aurreiritziak eta estereotipoak pairatzen dituztelako sin duda hay mucha tarea por hacer y en todos los ámbitos

pequeña las mujeres aquí presentes y otras muchas que no están aquí pero aportan en su lucha del día a día nos ofrecen conocimientos herramientas implicación y saberes para poder hacerlo insisto

en elkarrekin podemos y gracias a la generosidad de todos los grupos hoy damos un paso para hacerlo

y construir desde el acuerdo un acuerdo imprescindible para que el trabajo salga adelante un acuerdo que insta a que el gobierno

que las mujeres y niñas con diversidad funcional puedan vivir de manera independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida en igualdad de condiciones con las demás personas

ejecución y evaluación de todas las políticas que se impulsan en todos los departamentos para ello se le insta también al gobierno a realizar una guía en torno a la transversalidad de género y la diversidad funcional en todas sus formas

en este parlamento como máximo en un año y medio la iniciativa insta al gobierno solicita al conjunto de las instituciones de euskadi y se compromete como institución el parlamento

mencionaba y por último asume el compromiso de colaboración con las asociaciones que trabajan en este campo tal y como marca la convención y tengo que decir

poner en el centro de esta cámara preocupaciones que son de todas y soluciones que logramos compartir entre todas preocupaciones que traemos porque somos conscientes de que es imprescindible hacer mejor las cosas

y para que nadie los ponga en el lugar de importancia que requieren desde nuestro grupo ponemos sobre la mesa el compromiso de hacer un seguimiento de cerca a este tema

en un cajón o en el tintero hoy damos un paso adelante para que las instituciones se ocupen de acciones imprescindibles si realmente queremos vivir mundos en los cuales todas las personas puedan ejercer

debemos de luchar por un mundo en el que seamos socialmente iguales humanamente diferentes

sí muchas gracias presidenta vamos

funcional hoy estoy satisfecha de que todos los grupos de esta cámara tanto el grupo proponente elkarrekin podemos como todos los grupos enmendantes el grupo nacionalista vasco el grupo socialista

a la que espero vote a favor también el grupo popular aunque no ha presentado enmienda

el voto favorable de todos los grupos de esta cámara este acuerdo nos va a permitir avanzar en igualdad el concepto de niñas y mujeres con diversidad funcional abarca a mujeres y niñas con cualquier discapacidad o deficiencia física

auditiva mental con dificultades de aprendizaje cualquiera que sea la gravedad de su discapacidad sus preferencias sexuales su entorno cultural su edad residan en áreas rurales o urbanas

estamos hablando de una discriminación múltiple por un lado

la discapacidad funcional que padecen esas niñas y mujeres a la que pueden añadirse otros factores discriminatorios como raza preferencias sexuales etcétera la mujer con diversidad funcional es considerada

y además mucho más vulnerable para sufrir exclusión social no limitándose exclusivamente a la existencia de barreras arquitectónicas sino también

en que las personas con diversidad funcional ya sea física sensorial o psíquica

según encuestas realizadas de discapacidad efectuada en el año dos mil ocho un ocho coma cinco por ciento

una discapacidad de los cuales el cincuenta y nueve coma ocho es decir casi el sesenta por ciento eran mujeres y uno de los problemas que se han tenido

que han planteado muchas dificultades era precisamente esa dificultad de contar con estadísticas que pudieran facilitar datos que hicieran más visible la situación de discriminación que sufría este colectivo

en el umbral de la pobreza en españa y sufre mayores cotas de desempleo salarios inferiores mayores dificultades de acceso a servicios de salud mayores carencias educativas y dificultades en ocasiones para entender la información o mayor riesgo de sufrir abusos sexual o físico

política positiva dirigidas a conseguir eliminar esos prejuicios esos discursos actitudes y prácticas que impiden a las niñas

situación real y efectiva de igualdad de oportunidades en nuestra sociedad es importante tener en cuenta para ello documentos como el segundo manifiesto de las mujeres y niñas con discapacidad de la unión el plan integral de acción de mujeres con discapacidad o los indicadores de exclusión social de mujeres con discapacidad y por supuesto la convención sobre derechos de las personas

por parte del gobierno vasco una guía en torno a la diversidad de género y diversidad funcional en todas sus formas y en todas las políticas públicas

ha empezado a visibilizarse queda todavía mucho por hacer estoy de acuerdo con usted señora guanche mi grupo parlamentario los socialistas vascos somos conscientes de que como sociedad debemos luchar para conseguir esa transformación social

sin que por ello se le consideren menos capaces es muy habitual que las mujeres con discapacidad sobreprotegidas infantilizadas recluidas en el ámbito doméstico o en instituciones que las hace mucho más vulnerables a poder sufrir situaciones de violencia o agresiones sexuales y que en muchas ocasiones violan sus derechos fundamentales como seres humanos

sufren las personas con diversidad funcional no tiene que ver con la propia discapacidad sino con las barreras que la propia sociedad impone

habiendo sido una olvidada también de los medios de comunicación y durante mucho tiempo también incluso

tenemos que seguir trabajando para conseguirlo y por eso considero que los diferentes puntos que se recogen dentro de la enmienda transaccional que hemos firmado entre grupo nacionalistas vascos el grupo socialista el grupo elkarrekin podemos y el grupo de eh bildu un paso más para conseguir precisamente ese objetivo y dentro de la misma el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que continúe garantizando en el ámbito de sus competencias que esas mujeres y niñas con diversidad

en igualdad de condiciones reconociendo esa transversalización pero sobre todo que se le inste al gobierno vasco a realizar una guía

en todas sus formas y en todas las políticas públicas y que esa guía sea traída aquí al parlamento vasco en el plazo máximo de un año y seis meses es decir este es el plazo máximo no quiere decir obviamente que

a la mayor brevedad posible y además que se tenga en cuenta para realizar

esta guía el segundo manifiesto europeo de derechos de las mujeres y niñas con diversidad funcional la convención de los derechos de las personas con discapacidad y la guía que se elaborará

y que además se tenga en cuenta para ello tal cual marca la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad

de la perspectiva de mujeres y niñas con diversidad funcional y que participen también y puedan tener esa participación en la elaboración

acuerdo positivo y por ello estoy satisfecha nada más y muchas gracias

plan de atención a la diversidad programa de educación inclusiva ley y plan de servicios sociales

en centros especiales de empleo uno coma siete millónes para las ayudas a las empresas que faciliten la conciliación de la vida laboral y familiar setecientos mil euros a las ayudas para fomentar el empleo de las personas con discapacidad mercado ordinario de trabajo recursos económicos materiales y personales el trabajo y la inversión para las personas con diversidad funcional son

mis compañeras acabar con la invisibilidad de la diversidad funcional las mismas personas que tienen estas características explican que la mayoría de las veces es la propia sociedad la que no está preparada para ver a estas mujeres

niñas de igual a igual para tratarlas de igual a igual la discapacidad no es una característica del individuo sino que es el resultado de la interacción entre una persona con unas circunstancias personales concretas y un entorno que limita obstaculiza o le impide el ejercicio

en igualdad de condiciones que las demás algo que se agrava cuando son niñas o mujeres ellas pueden y ellas quieren no les cerremos las puertas

eskerrik asko presidente andrea sailburuak bueno creo que es un clamor que esta parlamentaria intente ser

y lo intentare obviamente por la hora y aparte porque creo que mis antecesoras

diversidad funcional es un término relativamente reciente a partir del dos mil cinco es cuando se empieza a utilizar este término y el término utilizada por la organización mundial de la salud

actividad y la restricciones de participación de determinadas

de incapacidades de diversidades funcionales hablamos de físicas intelectuales temporales permanentes sensoriales multisensoriales auditivas visuales incluso hablando de niveles hablamos de leves moderadas o severas

importante es respetar la condición de las personas con algún tipo de discapacidad sea del tipo que sea y sobre todo buscar la integración

el objeto ampliamente compartido y al fin al que se entienden que encomendar las distintas instituciones desplegando obviamente todas las competencias que tienen

de centros especiales hablamos de centros específicos de ayudas voy a hacer referencia también a un tema que me parece importante

especiales impulso a los centros especiales de empleo cuando hablamos de integración

hablamos del ocio hablamos del cuidado y la dependencia hablamos de accesibilidad y todas las barreras que pueden presentar estas personas yo por no extenderme más

lo compartimos por eso no adoptamos la decisión de enmendar la iniciativa original también esperábamos un acuerdo creo que el acuerdo es satisfactorio no me ve voy a extender más porque ya ha sido aquí ampliamente

y de arbitrar políticas públicas que sean utilices que sean efectivas para las personas

entre que va llegando la gente dos aclaraciones y dos deseos la primera aclaración

pero permítame que como parlamentaria me ocupe y me preocupe de lo que nos toca que son las políticas públicas segunda aclaración gracias

todas las medidas presupuestarias que se han desarrollado en el gobierno las conocemos y nos llama la atención que la cantidad más baja vaya orientada

de mayor normalización que es la del empleo ordinario creo que ahí tenemos un reto como sociedad como políticas públicas pero también tenemos este gobierno tiene un mandato parlamentario del inicio de esta legislatura que no se está cumpliendo y dos deseos el primero que en la ley de igualdad veamos la voluntad que hoy se ha visto aquí entre todos los grupos de la cámara

mujeres y de tantas mujeres diversas que tienen diversas necesidades que tienen que ser contempladas y el siguiente deseo que por una vez la igualdad deje de ser cosa de emakunde

de ser cosa exclusiva de la señora artolazabal porque ambas cosas son responsabilidad y deben ser tarea

hitz egiten nengoen bitartean esan diozu albokoari le voy a contestar le voy a contestar

ver el vaso medio vacío o medio lleno pues cambia un poco la perspectiva y

creo que no es nada objetivo se hacen cosas se harán cosas y esta vez creo que me deberían reconocer que de la iniciativa

a lo que hemos acordado no nos hemos dejado nada o creo que casi nada entonces bueno

munduko biztanleriaren ehuneko seizortziari eragiten diotenak por todo ello el parlamento vasco expresa su apoyo a todas las personas afectadas

es fundamental seguir garantizando el acceso en equidad a los medicamentos y productos sanitarios de uso vital para las enfermedades raras continuar con la identificación de pacientes

con la mejora en el acceso a prestaciones y servicios como la rehabilitación y la atención psicológica cartera común básica del sistema nacional de salud

y apoyando la creación de nuevos centros servicios y unidades de referencia para una asistencia multidisciplinar integrada

tras cuarenta y tres años de ocupación del sahara occidental y lucha

la situación sigue sin solucionarse y tanto la población residente

ven vulnerados sus derechos humanos viéndose obligados a vivir bajo la ocupación marroquí

por todo ello el parlamento vasco hace suya la declaración de palma en la que se

del pueblo saharaui así reconocido por la onu y la comunidad internacional reafirma de nuevo que la presencia marroquí en el sahara occidental es ilegal y que no puede tener efectos jurídico o políticos que menoscaben el derecho del pueblo saharaui a la